egun on guztioi en enero en este mismo año registramos ante esta cámara la proposición de ley relativa

de infracciones legales abusos de derecho y malas prácticas

el firme compromiso de elkarrekin podemos en la lucha contra el clientelismo y la corrupción pasa por seguir

esta lacra la sociedad vasca ha tomado conciencia en los últimos años del grave problema que supone la corrupción y el clientelismo también en euskadi donde su microclima no es ajeno a este tipo de prácticas como ya hemos dicho en anteriores ocasiones creemos que la participación ciudadana es uno

más eficaces que existen para exponer y combatir la corrupción política y como tal debe ser protegida y fomentada por los poderes públicos el beneficio potencial de aumentar las denuncias ciudadanas en materias donde a menudo opera la ley del silencio

establecer mecanismos de protección a las personas que realicen dichas denuncias a las que hemos denominado personas alertadoras según

no informaron de casos de corrupción siendo conocedores por miedo a represalias la comisión europea contempla

unos beneficios potenciales en la contratación pública de entre cinco mil ochocientos y nueve mil seiscientos millónes de euros anuales

y setenta mil millónes de euros de ingresos fiscales

la mitad de los casos de corrupción son denunciados por ciudadanos solo el diecinueve por ciento por grupos políticos por tanto parecía un objetivo alcanzable presentar una protección de ley en este parlamento sin embargo nos encontramos con que el gobierno manifestó

sorprendente daba las siguientes razones y leo uno

para dar curso a las informaciones relativas a hechos relacionados con posibles delitos contra la administración pública o infracciones administrativas

considera que el instrumento idóneo para proporcionar la incorporación de estas medidas a nuestro ordenamiento jurídico

sistemática y seguridad jurídica es la proposición de ley sobre transparencia y participación ciudadana sin embargo los grupos que sustentan al gobierno

una clara demostración de intenciones y sigue dos

todas las leyes que regulan el régimen de protección de las personas que suministran información relativa a hechos relacionados con posibles delitos contra la administración pública o con presuntas infracciones administrativas lo hacen en el marco de una regulación general sobre la transparencia del sector público la integridad institucional o las medidas o instrumentos a implantar en la lucha contra la corrupción con la

significativamente se aprobó con el voto contrario a nuestra formación le gusta mezclar churras con merinas porque ustedes hoy van a votar en contra de una proposición de ley que aunque parte del mismo

pero esta más ambiciosa y sin embargo esta directiva que como sabrán es de obligado

que el señor jáuregui del pse votó a favor como se ve en el acta y que el señor iturgaiz del pp vasco también junto con quinientos ochenta y ocho europarlamentarios solo veintinueve europarlamentarios votaron en contra como lo van a hacer hoy ustedes

ustedes y su coherencia traspuesta sigo con el tercer punto del criterio del gobierno en el criterio favorable que el gobierno emitió el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en relación a la proposición de ley que plantea la creación de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción

crear nuevos organismos públicos sin evaluar previamente el funcionamiento y el rendimiento

y articular la lucha contra la corrupción y estudiar con el debido rigor en qué medida los entes que se pretenden crear pueden resultar redundantes con las ya existentes generando duplicidades solapando regímenes

contra la corrupción en claro perjuicio de la cogerencia y efectividad

ha de ser reiterada en este momento puesto que la iniciativa que nos ocupa contempla la creación de un nuevo organismo público la de oficinas de alertas ciudadanas de euskadi al que se le asignan

y anticorrupción a la que se refería la citada proposición pues no nos parece excusa cuando ambas leyes

tal y como quieren hacer ustedes con la agencia de protección de datos y convertirla en la de transparencia en la ley que lleva su nombre

impulsora de la legislación europea en esta materia una asociación anticorrupción creada hace más de una década y que recoge desde su web un buzón de denuncias ciudadanas su trabajo permitió destapar caso como los papeles de miguel blesa

una iniciativa similar se está tramitando también en el parlament de cataluña con el apoyo de junts per cataluña esquerra republicana de cataluña en comú podem la cup y también el partido socialista de cataluña parlamentario el señor terrades defendió en su intervención

confidencialidad de los denunciantes y la protección efectiva de estos y por cierto tramitada conjuntamente con otra de ciudadanos

existencia de una ley de transparencia catalana y una oficina antifraude no son incompatibles nuestra ley establece la protección integral de las personas alertadores de infracciones contrarias al bien común por parte de las administraciones

e implanta canales seguros de alerta con la creación

que perfectamente como ya he dicho podría tratarse del observatorio hoy por hoy embargado

un régimen sancionador se aplica a todo el sector público vasco incluyendo también parlamento universidades

las infracciones son las que vienen establecidas desde europa y no desde castilla león relativas a corrupción política y añadimos cuestiones de contratación pública medioambientales

la ley recoge además una ley de derechos de las personas alertadoras como son el derecho a la seguridad a la indemnidad económica y laboral el derecho al anonimato el derecho a ser parte en el proceso o el derecho a la asistencia efectiva y asesoramiento jurídico también se establecen una serie de medidas de protección que consisten básicamente en no perder trabajos o en su caso contratos

y nuestra futura ley de transparencia no lo va a posibilitar tal y como ya lo he mencionado antes

con esta ley cualquiera puede alertar también a la oficina de alertas ciudadanas e incluso hacer denuncias públicas si lo anterior no ha funcionado los organismos

están bien pero es necesario que quien alerte sienta

protegidos porque es eso de lo que hoy estamos hablando de proteger derechos en conclusión presentamos una ley destinada principalmente a proteger a las personas que alertan personas como los denunciantes de pinosolo los del caso de miguel diego garteiz y ainhoa alberdi

aspectos turbios de la política y la contratación pública personas como roberto

son un fraude represalias por parte de quienes conocían la verdad pero no querían que se supiera o como el caso de izaskun obieta quien se ha prestado a colaborar en la investigación de las ope un varapalo por parte del viceconsejero como ya he dicho hemos trabajo con asociaciones y personas implicadas en la materia como simona levi

su propuesta en el congreso de los diputados donde la registraron el pasado treinta de mayo e imagino

que todos y todas las aquí presentes apoyamos en el parlamento europeo en vez de hacer uso de nuestro autogobierno de nuestras competencias y poder crear
más ambiciosa para euskadi sabrán ustedes qué tienen que esconder mila esker eskerrik asko macazaga andrea

erabiltzen du eta esaten du que detrás de una gran fortuna hay un gran crimen

baina badakit que detrás de una gran impunidad hay un montón de crimen eta uste dut hori dela

por entender que efectivamente la idea que se ha tratado de transmitir aquí con la creación

de las autoridades pertinentes la comisión de infracciones legales y cualquier otro tipo de delito

y no tenemos nada que ocultar usted nos ha dicho señora macazaga qué es lo que tenemos que ocultar para que esta proposición no salga adelante absolutamente nada

no es correcto no se ajusta a derecho y es prácticamente imposible por no decir del todo imposible en el trámite de las enmiendas darle forma necesaria para que esta figura funcione lo primero y en primer lugar y esa es la explicación del voto de abstención que hemos mostrado esta mañana desde mi grupo

tenemos que delimitar muy bien lo que son cuestiones administrativas de cuestiones penales los comportamientos que usted pretende que se denuncien en esta oficina son generalmente infracciones penales

en el ámbito de los tribunales de justicia y desde luego en el ámbito de la administración comportamientos que son o que pueden ser constitutivos de un ilícito penal de un delito sea un delito leve o sea un delito grave

ni investigados ni perseguidos ni instruidos por órganos que no sean jurisdiccionales simplemente por una cuestión porque el procedimiento penal tiene una serie de garantías que es absolutamente necesario que se cumplan para llevar a buen fin la instrucción y la sanción si es que corresponde ponerla por lo tanto la creación de una oficina administrativa para perseguir delitos penales no tiene ningún tipo de sentido ese

nos hemos abstenido porque eso es prácticamente por no decir del todo imposible

en una serie de enmiendas al texto que usted ha presentado usted quiere hacer extensivo sin ningún encaje dentro del estatuto ni en legislación estatal vigente quiere hacer extensivo este comportamiento en una oficina que dependería del parlamento y por tanto estaría

a todos los ámbitos institucionales de nuestra comunidad que tiene una serie de peculiaridades y tenemos tres niveles administrativos al menos fundamentales y

y el nivel de la administración general del nivel autonómico

al que controlamos nosotros cada uno de esos niveles tiene unos sistemas de control y tienen que ser independientes yo no encuentro encaje legal tampoco para colocar una oficina de tramitación que dependa de este parlamento que tenga que juzgar perseguir dar protección a asuntos que no concierne en absoluto a quien nosotros debemos controlar que es la administración general de la comunidad autónoma y no entiendo por qué

ese tipo de comportamientos dentro de otros niveles institucionales esos son los dos motivos fundamentales por los que entendemos que si bien la idea puede ser o no haber sido

aprobada dentro de la comisión europea tendrá que trasladarse dentro de un encaje jurídico correcto aquí

no es la situación inmediata la aprobación de este proyecto de ley porque no tiene entendemos visos de prosperar desde ningún punto de vista por

penal y por supuesto por su trampa competencial a la hora de pretender controlar comportamientos de unas administraciones que
no tienen por qué depender de este parlamento vasco muchas gracias eskerrik asko

socialista ha rechazado la toma en consideración de esta proposición de ley no porque no comparta la voluntad de proteger a quienes denuncian malas prácticas porque desde luego lo compartimos ni siquiera porque es reiterativa que desde luego lo es lo hemos rechazado porque no busca lo que dice pretender sino un titular

y porque representa una forma de hacer política y parlamentarismo del que discrepamos radicalmente porque si todo fuera tal y como se presenta y como se nos ha contado

el grupo proponente podría haber hecho un esfuerzo de trabajo en la tramitación de la ley de transparencia a través de sus enmiendas y buscando acuerdos para que salieran adelante pero no se está haciendo porque es una iniciativa que parte de los grupos que respaldamos al gobierno

y hay quienes entienden la oposición como bloqueo sin saber que sus votos pueden ser muy útiles para dar esa seguridad jurídica que dicen querer para los denunciantes si el afán fuera real

es su exclusiva responsabilidad la del proponente y desde febrero ha habido plenos suficientes para poder hacerlo pero se ha esperado se ha esperado a que se produzca determinada información que se decía no se iba a tocar

por detrás para pretender airear hoy aquí desde la claridad y contundencia con la que el grupo socialista rechaza cualquier intento de castigo a quienes tienen la valentía de denunciar prácticas fraudulentas y desde la coherencia que nos da haber sido quienes desde un gobierno socialista pusimos en manos de la fiscalía cada cuestión que suscitaban dudas y que han acabado en los juzgados décimos que hoy no se está impulsando

porque de forma añadida habrá que recordar que esta proposición se registró tres semanas después de que esta cámara diera a trámite con nuestro apoyo a otra análoga del grupo euskal herria bildu quizás elkarrekin podemos esperaba otra cosa y quizás le entraron sus habituales celos cuando otros de adelantan

junto con el pnv nos adelantamos con la proposición de la ley de transparencia en la que estamos esperando desde hace tres meses que elkarrekin podemos aclare su posición y euskal herria bildu se adelantó con una propuesta complementaria que ya contempla cosas como la que ahora se nos plantea y como ya dijimos teníamos que conseguir casar

mi grupo cree que ha pasado demasiado tiempo en esta legislatura como para que todos hayamos aprendido a situarnos en nuestros escaños a saber para qué estamos y para qué nos han elegido a saber cómo somos útiles y cómo sacamos las cosas adelante todo el mundo tiene derecho a presentar las iniciativas que quieran y todos tenemos el derecho de aceptarlas lo que hace falta es ofrecer argumentos si elkarrekin podemos quiere ser realmente útil en la protección de quienes denuncian malas prácticas en la administración pública puede decidir ya si quiere que terminemos la ley de transparencia y participación ciudadana

por la que nos regimos la que aprobó para toda españa el gobierno del partido popular

así que en contra de lo que se aparente con iniciativas como esta hoy elkarrekin podemos está siendo el grupo que más trabas está poniendo al reforzamiento de las políticas de transparencia y regeneración

queda por ver si en lo que queda de legislatura elkarrekin podemos quiere cerrar alguno para avanzar desde luego no escondemos nada y lecciones ni en esto ni en nada ni media

no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que agradezco la voluntad de elkarrekin podemos al brindarnos esta proposición de ley pero sinceramente

muy bien a qué viene porque entiendo que iniciativas reiteradas y reiterativas poco ayudan a la seguridad jurídica en materias tan sensibles como esta se trata de un texto poco articulado demasiado genérico

que una propuesta de transformación del marco normativo requiere de una solvencia que brilla por su ausencia pero les agradezco su voluntad su esfuerzo y su interés y les invito a que participen con mayor entusiasmo en las iniciativas que ya está examinando este parlamento

sería enormemente positivo que todos los grupos parlamentarios

leyes que en aras de la renovación de la confianza de los ciudadanos en la política adopten medidas que garanticen un marco de integridad institucional como eje central de la política de buena gobernanza para que entre otras cosas

queden desterradas de la vida pública estoy seguro también que todos estaremos de acuerdo en la conveniencia de una debida coordinación

porque en esta materia no partimos de cero algunas medidas que se dibujan en el texto que se somete a consideración se pueden integrar perfectamente

vigente en nuestra comunidad autónoma contamos con un dispositivo potente para promover la integridad impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas es más algunas de las ideas y preceptos

están siendo objeto de debate y transacción por los grupos parlamentarios

y participación ciudadana y pronto se verán también en la proposición de ley sobre la creación de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción presentada por eh bildu

que propone eh bildu nadaría en la redundancia en caso de aceptarse su idea de crear la oficina de alertas ciudadanas de euskadi o no estaríamos ante la ceremonia de la confusión y ante una merma de la seguridad jurídica que requiere todo ordenamiento jurídico

la proliferación de organismos y entidades además de duplicidad

no asegura una mayor utilidad en la batalla contra prácticas no deseables

no queremos adentrarnos en las motivaciones del grupo proponente para presentar la iniciativa sospecho que no se trata tanto de una motivación legisladora como mantener una llama mediática entorno a determinado asunto

gracias presidenta lehendakari consejero consejeras señorías

bien el pasado viernes treinta y uno de mayo interpelábamos a la señora consejera de salud en relación a las donaciones recibidas por el país vasco en las recientes iniciativas de la fundación

y sobre todo le interpelábamos y le preguntábamos por su alcance y la valoración

y yo tengo que decir que agradezco a la señora murga su información y su contestación a la interpelación está claro que fue satisfactorio comprobar

conocer el beneficio en calidad

y en renovación tecnológica para el tratamiento oncológico de la donación que esa donación representa sistema asistencial calidad renovación tecnológica en relación con la inversión en aparatos

para la compra de equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del cáncer

firmado entre el gobierno vasco y la fundación amancio ortega aquí en vitoria gasteiz en dos mil diecisiete

murga la renovación en un menor tiempo del previsto presupuestariamente de cinco aceleradores lineales para

y un mamógrafo equipos todos ellos de última generación serán para mejorar los resultados de salud en la calidad de vida de las personas que padecen cáncer en euskadi bien el sistema público vasco tiene diez aceleradores como también se recordaba lineales para la atención oncológica y gracias al acuerdo alcanzado se está pudiendo sustituir esos aceleradores e invertir las partidas destinadas a ese fin a otras infraestructuras sanitarias y eso es muy relevante eso es muy importante y eso también es avanzar y seguir avanzando en salud para todos los vascos es decir

en toda españa cerca de trescientos aceleradores lineales

mamógrafos donados por la fundación su precio puede llegar a los dos millónes de euros unidad pero no hay ceros suficientes

asistencial de esta tecnología y eso lo aseguraba recientemente una publicación periodística especializada al referirse a la acogida que han tenido donaciones por parte de la comunidad médica por parte de la comunidad profesional sanitaria en relación con estas iniciativas y con estas donaciones

tenemos que decir que han sido tradicionales o habituales las donaciones los

recientemente a instituciones asistenciales sanitarias hospitales maternidades universidades y siempre han existido

los mecenas pues en ese sentido benefactores y

a estas iniciativas sociales o sanitarias o de todo tipo culturales educativas

además de la que hoy nos ocupa la consejera informó también el pasado viernes de que en los últimos años

otro ejemplo han recibido cerca de uno millón de euros que se han materializado también por otras iniciativas y por otros donantes y por otras personas en distintas inversiones y en distintas compras o sea que eso desde luego que hay que reconocerlo y hay que agradecerlo no nos cabe ninguna duda por eso

consideramos que han sido tremendamente desafortunadas

en plena campaña electoral de algunos dirigentes políticos

y acusando injustamente a quien las hizo esas descalificaciones

y han sido perfectamente contestadas por la inmensa mayoría de la comunidad profesional

han sido contestadas todas esas descalificaciones con sentidos testimonios que todos hemos

de los procesos de los diagnósticos médicos que han podido recibir gracias a las nuevas infraestructuras sanitarias o que los han podido recibir antes o que les han podido recibir en mejores condiciones y eso es lo que verdaderamente ha descalificado

insultos y ha contestado todas esas descalificaciones como recordábamos en la interpelación

las muestras de gratitud y de valoración de lo donado

técnica de lo donado por parte de profesionales de la salud sociedades científicas

o la de hematología por colegios profesionales por asociaciones de pacientes por sindicatos profesionales por autoridades sanitarias hemos visto

responsables de comunidades autónomas sanitarios valorando y dando una calidad a lo que desde luego habíamos recibido en relación con lo que iba a ser

en nuestra atención sanitaria y eso es lo que nosotros tenemos que valorar en el parlamento como responsables y como representantes de la ciudadanía y hacérselo ver a quienes han

además otra de las cuestiones cómo se ha hecho la donación pues de una forma colaborativa estrictamente colaborativa

para que nadie la ponga en duda ha dependido además de las necesidades

y de los servicios de salud a los que se ha ofrecido y se ha ofrecido acordar la tecnología oncológica que más hacía falta en cada momento

ninguna donación se ha acordado se ha colaborado se ha cooperado con la sanidad pública en relación con estas cuestiones en este caso

es decir estamos ante una magnífica noticia para la sociedad pero para cualquier consejero consejera de sanidad

para todos parece que menos para alguno pero para toda la sociedad en relación con los niveles con la mejora en la asistencia sanitaria es por tanto normal que las ciudadanas que los ciudadanos agradecer a quien nos beneficia a sus esfuerzos y sus donaciones y por ello es bueno que el parlamento vasco agradezca y reconozca estos gestos tan importantes porque son muy importantes y ya hemos hablado de las cantidades

de calidad y de asistencia sanitaria actuaciones que además como ya se nos ha dicho también pueden seguir sosteniéndose

sanitaria u oncológica o en otras materias como desde la fundación amancio ortega se ha anunciado que se mantendrá su política de donaciones o sea que eso también sigue siendo una buena noticia

bien los grupos han presentado enmiendas a la moción que presentábamos y tengo que decir que comparto esencialmente va a ser la base de

que presentaban los grupos que apoyan al gobierno supongo que se repartirá

en el último momento esta enmienda

en el reconocimiento y en el agradecimiento a quienes colaboran en esa lucha contra el cáncer está bien claro que es lo que yo hablaba antes

colaborativa y una donación transparente o sea que en ese sentido en este caso proyectada a la asistencia sanitaria oncológica o sea que en ese sentido

sin embargo no podíamos compartir el planteamiento que lógicamente los otros grupos las enmiendas que elkarrekin podemos eh bildu

por eso no era fácil acordar ni transar

planteaban otro debate otro debate completamente distinto al nuestro lo que planteaban las dos enmiendas era un debate distinto al que nosotros

que queríamos en nuestra moción y que hemos conseguido a través de la transacción pues nosotros queríamos agradecer

reconocer esencialmente las donaciones y qué querían los grupos enmendantes elkarrekin podemos eh bildu quieren desconfiar quieren basarse en la desconfianza y desviar la atención hacia temas nada tienen que ver en relación con el debate planteado no pues fundamentalmente

sobre la desconfianza bueno la enmienda de elkarrekin podemos quiere por un lado decir lo obvio

compartimos pero cuál es el factor de la enmienda de elkarrekin podemos

hablar de fraude fiscal hablar de elusión fiscal y de evasión fiscal pero por qué cuál es la razón de hablar de eso en una enmienda de estas características por qué hay alguna acusación de algo hay algún planteamiento que hay que hacer

es que es un tema es un tema fraude fiscal

se quiere acusar a alguien de algo no sé pues en ese caso yo creo que el planteamiento si

otro será el planteamiento otro serán seguramente los intervinientes el señor damborenea me suplirá efectivamente mucho mejor que yo en este debate y hablaran ustedes de fraude fiscal o de políticas fiscales pero en este tema de lo que nosotros estábamos hablando de agradecer a los que nos hacen avanzar en calidad asistencial

nada que ver pero bueno ya sé que uno de los hilos conductores en campaña fue ese mezclando determinadas cuestiones en ese debate que abrieron injustamente bueno la pretensión era desprestigiar y con la estrategia de verbal simplona

en malo y eso es imposible pero sobre todo es injusto y eh bildu también hacía un planteamiento de política fiscal pues no sé difícil incomprensible

hablando hablábamos de donaciones no estamos hablando de un puesto no estábamos de otra cosa estábamos hablando de donaciones a la sanidad pública vasca

avance con la mejora con la mejor atención con la más atención

gracias a esas donaciones en otras inversiones y en otras infraestructuras sanitarias y agradecer y reconocer no estábamos hablando de impuestos

porque desde luego tendremos opinión sobre ese asunto y por otro lado eh bildu reclama un protocolo de donaciones ahí está metido en este tema la desconfianza cuando es algo que está perfectamente regulado en la normativa de todo tipo contemplada en nuestra ley de patrimonio

además también antes me refería a ello la iniciativa para

fijado qué objetivos tenga habla del objetivo de la transparencia y

con la donación de la fundación amancio ortega se cumplen al máximo algunos de los objetivos aparte de la eficacia y de la posibilidad de mejorar en la asistencia

hemos estado informados perfectamente y permanentemente del dinero de los acuerdos de los firmantes de las infraestructuras del destino de los fondos para qué para cinco aceleradores lineales de radioterapia para un mamógrafo de última generación

además de que eso puede ser sostenido en el tiempo más transparencia que eso en relación con un

en la recepción por parte del gobierno vasco están perfectamente reguladas en nuestra normativa pues yo creo que no es necesario o sea no es necesario y es también desviar la atención y decir hacer protocolos porque hay donaciones que pueden ser irregulares no señora

que responden a los criterios y a la normativa de la ley de patrimonio de euskadi ponente en su momento y en ese sentido pues yo creo que ahí se cumplen todas esas premisas y no hay que desconfiar

donaciones de la fundación amancio ortega como otras tantas de las que ya habló la señora murga el otro día han sido muy beneficiosas para la salud de los vascos y para el perfeccionamiento de nuestro sistema sanitario y rechazamos como lo ha hecho la inmensa mayoría de la comunidad sanitaria las descalificaciones e insultos vertidos por políticos en campaña

además de crear miles de empleos pues además destine su dinero

a la sanidad a la oncología a los servicios sociales públicos esa actitud decíamos el otro día merece agradecimiento merece reconocimiento merece hasta homenajes no insultos efectivamente hemos firmado una enmienda de transacción y

con los grupos que apoyan al gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

consejera compañeros y compañeras parlamentarios el compañero barrio ha aplicado la política de a caballo regalado no le mires el diente

parlamento es cierto que esto no es un tema de campaña electoral

para hablar con sosiego en el parlamento y en las comisiones en los colectivos profesionales

que viven los problemas de la tecnología en el sistema sanitario público

voy a intentar en diez puntos muy sintéticos explicar por qué elkarrekin podemos estamos en contra de la moción que se ha transaccionado

ello significa impuestos suficientes y una recaudación progresiva situación que no se da en nuestro país

es conocido el diferencial siete u ocho puntos por debajo de la presión fiscal del promedio de la unión europea se ha hablado largamente del tema más de diez puntos

fundamentalmente se produce este diferencial a costa de una baja de tributación de las grandes fortunas del país no parece recomendable

y los pensionistas algunos pensionistas pueden superar el veinte por ciento de su irpf segundo las donaciones

gozan de unas ventajas fiscales que vienen a rondar una desgravación entorno al treinta por ciento de lo donado no nos afecta a los vascos que tenemos otro modelo fiscal y

de manera que una tercera parte de esas donaciones aproximadamente

de los trescientos nueve millónes de euros donados estamos hablando de entre ciento ocho y ciento veintitrés millónes de euros

es un gasto público tercero qué sucede con esta cuestión en el ámbito internacional las donaciones privadas

moderada o baja con servicios públicos insuficientes en cobertura y medios

de trump han sido seguidas por un aumento exponencial de las donaciones privadas

y medios suficientes así como una importante presión fiscal de carácter progresivo

nórdicos las donaciones privadas apenas se dirigen a programas de ayuda internacional

cuál es el modelo de sociedad que queremos el apoyo a las donaciones viene de la mano de los partidos neoliberales de los grupos empresariales y de los grupos mediáticos

las donaciones han sido condicionadas no es cierto que han sido colaborativas han sido condicionadas y han sido finalistas a la tecnología para el tratamiento del cáncer

por lo tanto los intereses del donante han predominado en los convenios firmados en las quince comunidades autónomas

no se han considerado los intereses generales del sistema sanitario ni las necesidades de salud

es peligroso que particulares puedan entrometerse en las políticas de organización planificación y gestión de los recursos de la sanidad pública se condicionan

quinto no parece que son tan evidentes las necesidades del equipamiento tecnológico de nuestra sanidad pública según la oecd health data dos mil dieciocho en el estado español hay diecisiete

por millón de habitantes y dieciocho equipos tac

por millón de habitantes en el reino unido siete coma dos equipos de resonancia nueve coma cinco equipos de tac en canadá nueve coma cinco

quince equipos de tac en suecia once coma uno equipos de resonancia catorce equipos de tac con carácter general encontramos

más profundamente neoliberales la tecnología y la inversión en tecnología es muy importante por ejemplo en estados unidos hay treinta y seis punto siete equipos de resonancia magnética por millón de habitante cuarenta y uno punto ocho equipos de tac

estos datos de existencia de tecnología en distintos países del mundo

no tiene que ver con mortalidad por cáncer no tiene que ver con mortalidad general

no es cierto que la inversión en tecnología tenga una relación directa con los indicadores de salud

hay un problema de baja utilización de tecnología en el sector público contrasta mucho con el uso de tecnología disponible en el sector privado

no es un tema de aparatos es un tema de personal para poner una acelerador lineal

hace falta permiso del consejo de seguridad nuclear y sobre todo hace falta personal cualificado suficiente cuántas veces hemos encontrado

y a la tarde están cerrados a eso no llamamos un uso intensivo del equipamiento disponible a eso no llamamos optimización de los recursos tecnológicos en nuestro caso en nuestros hospitales conocemos que los equipos de acelerador lineal trabajan de ocho

no es problema pero no otros equipos ecogardiogramas mamógrafos ecógrafos

que se cierra por la tarde existe

una sobreutilización de la tecnología sanitaria la cultura de la tecnología sanitaria tiene que ver con el mercado

es mentira no con las necesidades de salud tiene que ver con los intereses del mercado y con los intereses de venta fundamentalmente de productos los periodos de amortización de la tecnología sanitaria cada vez son más cortos para renovar cada vez más rápido

que existe una sobreutilización de la tecnología sanitaria hay una cultura y una práctica clínica que tiene que ver con utilización de tecnología diagnóstico y tratamiento como elemento central

el médico no me mira según diversos estudios en europa se estima que

no está justificado o sea más tecnología no es más salud aún más más tecnología en algunos países se ha demostrado que es

las donaciones del sistema sanitario deben garantizarse por los impuestos lo que precisa un cambio del sistema fiscal que asegure la continuación progresiva de todas las personas una vez se garantice esta equidad fiscal que aseguren la contribución

a la sanidad pública siempre que sea incondicionada y pueda ser utilizada por las administraciones públicas de acuerdo con las necesidades detectadas y los planes de salud que

en equipamientos en personal en infraestructuras etcétera etcétera

sí la lógica del mercado tenemos que utilizar los recursos tecnológicos existentes en la sanidad pública de una manera intensiva para lo que se necesita

y no necesariamente más aparatos y además deberíamos avanzar en medidas preventivas y estrategias de promoción de salud que favorecen la desmedicalización de la sociedad

de salud solamente un apunte para acabar en mil novecientos setenta y ocho

quebró el hospital de basurto yo estuve en una manifestación que me detuvo la policía

porque el hospital de basurto era de beneficencia y el gobierno vasco decidió hacerlo público

quebró las donaciones como usted bien dijo es el inicio de los sistemas de salud en el mundo siglo diecinueve principios del veinte donde no había cultura de derechos

entonces las donaciones la beneficencia privada

no solamente en basurto los hospitales de triano en la maternidad

no había derechos pero ahora sí hay derechos y hasta que el hospital de basurto

y entraron en el sistema público no pudieron levantar cabeza y eso hay que decirlo también eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

en euskal herria bildu tenemos claro que las inversiones en servicios públicos tan fundamentales como la salud o la educación por ejemplo no pueden ni deben estar al albur de la voluntad de donantes privados toda persona que quiera contribuir al reparto de la riqueza está en su derecho de hacerlo

eso no significa que la administración pública pueda dejar un derecho fundamental al dictamen de los caprichos de unos pocos defendemos un modelo redistributivo un modelo que funciona basado en la solidaridad en la justicia

en esto la administración debe decidir en qué emplea el dinero sin injerencia ninguna

tecnología en nuestros hospitales pero esto debería ser ya per sé por medio de los presupuestos públicos porque alguien se imagina en cualquiera de nuestras casas que el pan dependiera

de que nos lo donase el panadero o el carnicero de turno seguro que no

cuando en este país cuando en este país se saca pecho defendiendo una sanidad pública para todos y para todas

a todos es poner los medios suficientes desde nuestros ámbitos de responsabilidad y esa es la obligación del gobierno asegurarse de medios económicos suficientes

esa mejor sanidad que todos y todas queremos y para eso están los impuestos sería muchísimo más interesante convencer a inditex para que traslade su sede fiscal

anual miren preparando esta intervención

así envejece la sanidad en madrid el cuarenta por ciento de las máquinas de alta tecnología tienen más de diez años

ya lo sé ya sé que no vivo en madrid porque no querría pero es un ejemplo claro de un modelo de gestión pública de una comunidad gobernada durante muchísimos años por el partido del proponente de esta moción

de dejación de funciones de un gobierno que sin duda alguna decía que no tenía para más que si la crisis que si las prioridades de gobierno que si no había dinero para mucho más le suenan esas a mí sí a mí me suena

y en definitiva esto se trata de las consecuencias directas en la calidad de la sanidad pública de un gobierno con un modelo concreto de gestión pública reflejo de un modelo económico y de un modelo social un modelo en el que los ricos pagan pocos o ningún impuesto donde los ricos se financian su propia sanidad privada y donde los ricos si consideran oportuno

para los demás eso sí con jugosas desgravaciones fiscales que les pagamos entre todas las ciudadanas y ciudadanos del país un modelo de paraíso fiscal en definitiva

como leí una vez que denominaban unos economistas a la comunidad de madrid un modelo que no es el que queremos para nuestro país en definitiva y para nuestra unos datos miren el señor amancio ortega que luego resulta que en su transaccional

ha desaparecido por mucho que el señor proponente tenía un interés especial pero ha desaparecido

solo en dividendos solo en dividendos de inditex ya de lo demás ya hablaremos mil cuatrocientos millónes de euros yo no sé dónde tributa el señor ortega

no sé si tributa en madrid o en galicia pero me da igual en uno o en otro paga cero de impuesto de patrimonio cero

y la inversión que ustedes quieren poner en loas

y demás no llegan ni a los veinte y aquí en el caso por ejemplo de gipuzkoa si se hubiera mantenido vivo el impuesto de grandes fortunas que tantos quebraderos

hubiera pagado casi noventa y cuatro millónes de euros por comparar noventa y cuatro millónes de euros que hubieran

y que se hubieran distribuido como los representantes y las representantes de la ciudadanía hubieran decidido y de eso estamos tratando hoy aquí

o si queremos seguir dependiendo de la limosna dominical

nuestra apuesta en euskal herria bildu es clara dotémonos de un sistema fiscal adecuado para ello

un sistema redistributivo porque los ricos lo que tienen que hacer es pagar los impuestos que les corresponden sin subterfugios de elusión

por aportar a la sociedad lo que deben como hacemos el resto de la ciudadanía

el objetivo fundamental de toda administración pública que es unos servicios públicos de calidad para todos y para todas y esto no es un eslogan esto es una declaración de principios

que cuando llegues al final de tu cuerda hagas un nudo y aguantes pues de eso se trata

todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas aportemos en función

sin aplausos y sin loas que no llevan a ningún sitio

zintzotasunez y no me vengan luego con la tradición de las donaciones y los legados de nuestro país

estamos hablando de derechos estamos hablando de justicia social y de igualdad y no de caridad ya dejamos atrás esas sociedades décimonónicas donde las acaudaladas familias del país financiaban hospitales

con escasa participación es verdad de las administraciones públicas de la época pero los trabajadores y las trabajadoras en aquel momento carecían de derechos sociales y laborales y a eso nosotras no estamos dispuestos a volver esan bezala eta bukatzera noa presidentea

respondiendo un poco a las intervenciones tanto del señor uria como de la señora pinedo

eh bildu que no podemos hacer política dependiendo de la limosna un presupuesto del gobierno vasco que supera

el departamento de la señora murga supera los tres mil ochocientos millónes de euros

y está usted diciendo que la política de salud del gobierno vasco depende de la donación del señor amancio ortega hombre

donde por cierto se aceptó la donación del señor amancio ortega y además se habló

de lo que suponía para los pacientes valencianos no es incompatible pagar impuestos con tener responsabilidad social porque no es incompatible aquí quienes estamos apoyando la iniciativa planteada por el señor carmelo barrio no estamos diciendo que el señor amancio ortega o quien quiera hacer donaciones

vinculada a oncología deje de pagar impuestos no sé para qué no estamos diciendo eso estamos diciendo que es compatible el pago de los impuestos con tener responsabilidad social

las empresas pagan sus impuestos al mismo tiempo que tienen un compromiso con la sociedad y entendemos que esto no se puede negar porque

que se beneficiarán de la nueva tecnología a través de la donación del señor amancio ortega

la utilicen qué no se beneficien no señora pinedo porque es lo que usted ha venido a intentar que parezca que algunos defendemos a unos defraudadores no sabemos a quién y que preferimos aceptar unas donaciones sin hacer la política fiscal que tenemos que hacer el partido socialista defiende como parece que ustedes el blindaje del sistema público de salud que garantiza el derecho a la salud universal de todas las personas

cuando llegue el debate de los presupuestos a ver si ustedes toman a bien negociarlo y alguna vez apoyarlo para que también los pacientes de oncología pueden beneficiarse de sus apuestas

sobre la que hablar después de otras cuestiones como las donaciones que vaya por delante mi grupo agradece esa base para nosotros es fundamental

a veces esto se olvida el señor barrio ya anunció en su interpelación en aquel pleno de control que traía esta moción también para que nos retratemos ante un hecho que por cierto

equivocada y desafortunada hay que tener cuidado con la posibilidad de poner en riesgo los ejes que constituyen las líneas determinantes del sistema público

un plan de desmantelamiento de los pilares fundamentales de ese sistema público de salud que ha sido

la mayor transformación social pilares todos ellos por cierto en los que los socialistas hemos tenido mucho que decir yo creo que esto no se nos ha olvidado aunque parece a veces que nos gusta utilizar determinados debates para aparecer unos como los grandes defensores de la progresividad de la fiscalidad

y nada más lejos de la realidad y es verdad como también recordó la consejera en la interpelación de hace dos semanas

que han hecho posible contar con una red asistencial en materia sanitaria puse de ejemplo el hospital de basurto que también nos ha hablado el señor uria

a partir de lo que se le iba cediendo y lo que ocurrió cuando tuvimos un estatuto fue empezar a trabajar para que la salud dejara de ser caritativa y pasara a ser un derecho así que una vez que en mil novecientos ochenta y siete por cierto con un consejero socialista

un sistema público que garantizara a toda persona el derecho a ser atendida pero es evidente que las dificultades presupuestarias del pasado

acaso no hay que intervenir en tecnología no hay que intervenir

que no se puede unir el desarrollo tecnológico a los resultados en temas de salud yo no sé si se pueden unir o no probablemente de esto sabe usted más que yo

que invertir en tecnología nos quedamos como estamos y dedicamos esas inversiones a qué yo desde luego en este punto discrepo de usted

tal y como insistía el gobierno socialista pero no lo fue entonces con todo diseñamos un plan estratégico

que el siguiente gobierno asumió y que esta cámara ratificó por unanimidad en el año dos mil trece y ahí se contempla la necesidad de renovación tecnológica

que coincidían con un aumento exponencial de la población que requiere de material de extraordinaria precisión que la fundación amancio ortega se haya implicado en ese esfuerzo para los socialistas es una gran noticia lo es para quienes ya han podido acelerar sus tratamientos

en el futuro así que al señor barrio le décimos que sí que desde luego agradecemos a esta fundación que en el uso

tras cumplir con sus obligaciones fiscales porque no queremos eximir

destine parte de ellos a la sanidad pública porque es cierto que también podría haber hecho esa inversión a centros privados

las comunidades autónomas también en comunidades autónomas donde no gobierna el partido nacionalista vasco con el partido socialista

a usted en temas ideológicos y que desde luego firmaron el convenio lo agradecieron lo aceptaron aunque luego se vayan a vivir a otro lado para evitar otro tipo de problemas así que vamos hacer todo en conjunto creo que debemos prestigiar nuestro sistema público de salud que es fruto de una vocación política para impedir que este derecho

una fiscalidad justa y progresiva y de forma complementaria es de agradecer toda colaboración privada

aporte a lo público sea la fundación amancio ortega que es de la que estamos hablando hoy probablemente porque el montante presupuestario es muy importante sea greenpeace que lo ha hecho en otras ocasiones sea cáritas el banco de alimentos amnistía internacional porque las donaciones no solo vienen de manos de amancio

una función pública que en ningún caso puede sustituir la responsabilidad de las administraciones en garantizar los derechos en este caso

lo que hacen todas ellas es llegar allí donde se está produciendo algún tipo de carencia y junto al agradecimiento por su labor debe ir siempre la apuesta política decidida

creemos que es importante aceptar esas donaciones teniendo en cuenta cuál es la responsabilidad y el compromiso que adquiere un gobierno teniendo también en cuenta los datos presupuestarios

cuando el departamento de salud tiene el treinta y tres por ciento del presupuesto de la comunidad autónoma hablar de que hacemos política o que pretendemos hacerlo

pues yo creo que es un poco tergiversar el debate una cosa es ser capaces de aceptar las donaciones de entidades privadas por supuesto obligando al cumplimiento de la ley

porque ustedes no han sustentado el no a la votación de esta iniciativa

decirlo y entonces la conclusión a la que llego es que podemos va a decir no porque es una donación condicionada porque viene de españa porque la fiscalidad

porque le parece una intromisión que llegue esta donación a la salud pública vasca y porque considera que lo de invertir en tecnología bueno pues que estamos invirtiendo demasiado y que causa efecto parece que no hay pues mire decirles que desde luego creo que la responsabilidad está en la política y en la administración pública creo que tenemos un sistema público de salud en el que otras comunidades autónomas se miran otras que por cierto también aceptan las donaciones del señor amancio ortega pero todo lo que sea aportar para mejorar en los tratamientos

aceptarlo y centrémonos en el debate y hablemos de lo que hay que hablar y ahora empezamos el trabajo para preparar el próximo proyecto presupuestario a ver si ustedes se lo toman tan en serio y no vienen seis meses después a darnos lecciones de lo que el presupuesto tiene que decir

siéntense negocien y no mareen para acabar votando que no nada más muchas gracias

egin den adierazpen hori como que este gobierno ha aplicado el refrán que dice a caballo regalado no le mires el diente yo no tengo claro que si ustedes hubieran estado en una posición de responsabilidad

se ofrece por parte de la fundación amancio ortega esta donación rechazado no lo tengo nada claro no lo tengo nada claro

y tampoco me gusta eso de mezclar el debate fiscalidad a nivel estatal con la situación aquí en euskadi etcétera es que

de lo que es el tema principal de este debate el señor uria se ha referido ha hecho un análisis basado en unas fuentes desconocidas en datos obtenidos en fuentes desconocidas que sin ánimo de ser impertinente le agradecería que nos las citara para poder contrastarlas y en futuro debate que quizás en ese momento sí que entraremos a debatir sobre el tema de la fiscalidad

y sacar conclusiones al respecto ha hecho la afirmación de que en países con presión fiscal baja es donde se hacen más donaciones lo desconozco no lo sé lo que sí sabemos es que en países que usted ha citado como los países escandinavos en suecia por ejemplo instituto karolinska las principales donaciones las recibe de una multinacional como ikea

entonces esas afirmaciones que ha hecho no las compartimos en cualquier caso

políticas ideológicas etcétera que habría que contrastar

tenido en cuenta las necesidades del sistema sanitario no por lo menos en euskadi no sé si se refería a euskadi o estaba hablando también a nivel estatal el convenio que se firmó con la fundación amancio ortega

las dos partes hicieron aportaciones y se acordó una serie de

en función de las necesidades que existían y que por cierto esa donación

ez du dohaintzat bakarrik cualquier tipo de adquisición por parte de la administración pública tanto a título oneroso como a título gratuito

baieztapen horrekin debe garantizarse una equidad fiscal y entonces las donaciones estarían bien pero

nosotros entendemos que ya se está haciendo eso ya se está haciendo eso entendemos que es así

entendemos que se está haciendo así eta eh bilduren kasuan ere ez

direnik con buscar y promover un sistema fiscal justo progresivo equitativo eta abar

el acuerdo al que hemos alcanzado y el discurso también que ha apuntalado también cosas importantes de lo que era la intervención inicial

que las donaciones tal y como ha hecho usted el discurso son un retroceso para la sanidad o sea las donaciones usted

lo que ha pasado en estos dos últimos años y lo que supone la tecnología

vamos a ver el discurso que usted ha hecho desde luego yo creo que

ese sí que empobrece la sanidad pública ese sí que empobrece porque ha dicho

recordar que son curiosas pero mire no era un debate fiscal usted ha querido llevar el tema

y eso es cumplir con la fiscalidad pero en cualquier caso es un beneficio para millónes

de euros para miles de personas eso es lo que es de verdad esta cuestión yo no he oído a ningún responsable de hacienda pública de ningún sitio rechazar esas donaciones de ningún sitio no algún agujero negro fiscal ha dicho usted ha hablado de un agujero negro fiscal es que ha sido

desde luego sí que le tengo que decir que han sido colaborativas en euskadi han sido perfectamente colaborativa y trasparente y lo hemos visto y eso es lo bueno es decir

amancio ortega ha querido poner por delante en relación con ese asunto

y luego como siempre la hostilidad esa hostilidad permanente a la colaboración público privada esa hostilidad permanente vamos a ver pero si la colaboración público privada y aquí en euskadi

apuntalar la sanidad pública y los servicios públicos enriquecerlos garantizarlos extenderlos promoverlos eso es lo que hace la colaboración público

el ejemplo lo tenemos en este país y luego la otra palabra claro tenía que llegar la palabra neoliberal

no me gusta a mí que soy de izquierdas pues lo demás es neoliberal

que tienen tratamiento o diagnóstico o que anticipan su tratamiento o que mejoran su tratamiento a ver si es una estrategia neoliberal el hecho de aprovechar las oportunidades que se lo digan señor uria a ver si es una estrategia neoliberal y usted sabe que no que usted es solo fácil yo leía

cuando se hizo el convenio con la fundación ortega y lo primero que venía la palabra políticas y estrategias neoliberales pues bueno pues está bien claro que eso le sirve a ustedes en todo los debates

más tecnología no es salud más tecnología sanitaria no es salud pero vamos a ver cómo que no es salud más tecnología más ciencia más investigación

cuando fueron inventados descubiertos y promovidos y cuando se empezaron a extender no es eso más salud es que todos los discursos

no se puede hacer un discurso tan catastrofista y además como le ha dicho alguien no le veo a usted de consejero de salud y diciendo

que no a las donaciones a la tecnología sanitaria que afecta a la salud de más personas que garantiza mejores y más tratamientos no le veo que no o sea que un discurso ciertamente me ha decepcionado un poco porque yo creo es empobrecedor de la sanidad pública

porque es una oportunidad lo que se tiene es una oportunidad y aquí no se puede apuntalar los discursos como los suyos en la desconfianza en la desconfianza permanente de los que quieren que colaborar de los que tienen sus negocios de los que tienen sus éxitos empresariales y los que luego quieren colaborar con la sociedad

todo lo demás es usurpador de espacios públicos

así no es es decir y además y además ya si el señor uria decía que más tecnología no es más salud la señora

esas máquinas esas máquinas a los aceleradores

para los tratamientos oncológicos ha dicho a dicho máquinas compruébelo máquinas máquinas lo ha dicho compruébelo compruébelo compruébelo ha dicho esas máquinas no señora no son máquinas

última tecnología tecnología de última generación para mejor salud y para más salud eso es lo que es es decir es que aquí les vale el discurso descalificador

es aprovechar las oportunidades y eso es lo que hacemos y qué hacemos

hace sobre la materia fiscal que lo quiere mezclar con todo esto hablando de la ley de patrimonio a ver qué pasó cuando bildu impuso el impuesto de patrimonio

pagando sus impuestos en otro lado esos fueron los éxitos de bildu en relación con la gestión

vamos a centrarnos vamos a agradecer a los donantes

como beneficiarios de la sanidad pública de ese paso adelante que se ha dado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

bakartxo tejeria andrea consejeros consejeras

porque el tema es complejo no solamente es complejo sino que además de ser complejo el papel de la tecnología en un sistema sanitario los intereses de los pacientes

los intereses de las multinacionales fíjense que se mezclan un montón de intereses por lo tanto es fácil hacer un discurso

paternalista pobres pacientes del cáncer insolidario con un tema que es difícil de tratar yo he hecho un esfuerzo de sencillez en diez puntos y creo que la mayoría me ha entendido voy a repasar algunos asuntos

es obvio que las políticas sociales tienen que ver

yo creo que no hay nadie en este parlamento ni siquiera el parlamentario damborenea que esté en contra de esto las políticas sociales tienen que ver con las políticas fiscales y dicen señor uria no mezcles cosas pero cómo que no mezcles cosas

no hay cultura de derechos sociales no hay extensión

impuestos adecuados y suficientes si no hay políticas progresivas

por lo tanto teníamos que hacer un esfuerzo de comprensión de cómo se comportan las presiones fiscales en distintos países del mundo y con distintos modelos de sociedad en relación con los sistemas de salud y cómo los que son más frágiles más débiles

como en estados unidos tienen presión fiscal baja y tienen donaciones altas

la ética protestante esto de la filantropía tenía que ver más con la ética la cultura protestante no es cierto la ética protestante se da en suecia en noruega en finlandia en dinamarca y no hay

o hay una filantropía como muy bien ha dicho el compañero orbegozo ligada a programas de ayudas sociales no lo ha dicho pero lo digo yo por lo tanto

los modelos de sociedad con políticas públicas potentes no tienen donaciones privadas potentes

digan lo que digan expliquen lo que expliquen yo sé que el compañero barrio tiene buena intención cuando habla de estas cosas y no entiende ser neoliberal ya se lo explico yo con mucho cariño

y a ver quién me da pasta para sobrevivir los derechos sociales son de amplia cobertura y de calidad en sus prestaciones

son un problema de salud es un problema de salud las desigualdades en salud esta es la segunda reflexión la tercera reflexión compañero y amigo me pide fuentes y datos bueno pues nada vamos a darlas todos vamos a dar fuentes y datos yo solamente he dado una fuente oecd

que habla de la relación de equipamientos por millón de habitantes de varios países que me han parecido significativos

hay una corriente crítica en el mundo profesional sin ninguna duda en el mundo intelectual y en el mundo político que plantea

con el uso irresponsable de la tecnología en los sistemas sanitarios

hablamos cuando quiera comemos cuando quiera discutimos cuando quiera

colectivos de profesionales que levantan la mano y dicen el uso indiscriminado

no siempre a los pacientes y sin duda

compañero barrio más inversión en tecnología de forma indiscriminada para hacer ofertas indiscriminadas de prestaciones sanitarias no es más salud a veces

a veces es más peligroso tercera causa de muerte en estados unidos eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

yo entiendo que ustedes querían un debate bueno no sé cómo decirlo sin

vacuo sobre orlas fotos y demás pero es que si ustedes hablan de donaciones a la administración pública

de la financiación pública estamos hablando de impuestos

y señor barrio máquinas es que son máquinas o no son máquinas son plantas son máquinas señor barrio máquinas y lo he dicho en mi intervención inicial no utilicen el dolor de la gente no utilicen las esperanzas de las familias y eso es lo que ha hecho usted señor barrio y eso es muy feo sobre todo porque yo no he dicho absolutamente nada de lo que usted y la señora rojo

de argumento yo no he dicho que no se reciban las donaciones en ningún momento he dicho

a la administración pública que la haga no hay ningún problema yo no he dicho que no se haga pero tiene que sacarse el señor lehendakari una foto

con un donante que tiene detrás una marca comercial y auspiciar una campaña comercial gratis del señor lehendakari de vedad tenemos que tener una foto

con todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad vasca porque en esta comunidad claro que somos generosos pero una cosa es ser generoso y otra cosa es buscar

ha utilizado usted a las familias y yo no voy a hacer eso porque lo he dicho en mi primera intervención pero una cosa es muy sencilla si usted dice

no tiene presupuesto para comprar máquinas porque se ha decidido que no había dinero para más o que las

y déjense de utilizar el dolor de las familias que todos y cada uno de nosotros podemos estar en esa misma situación y no quiero aquí personalizar mire

ni una sola vez yo he dicho que cada uno pague lo que debe pague lo que debe lo que pasa es que lo que debe dependiendo de quién ponga las normas es cero

o diez y ustedes son los del diez ese es el problema y ustedes no creen

no creen ustedes creen en un sector público cuanto más pequeño y que aquellos que tengan dinero se financien su sanidad privada se financien su educación privada y los pobres obreros y obreras ya haremos alguna cosita para que no se mueran del todo

de la derecha señor barrio y no estamos hablando de eso estamos hablando en el siglo veintiuno estamos hablando de derechos sociales y de justicia social y lo que no puede ser

dependan de los caprichos de los ricos y de las ricas porque usted ha dicho que hay gente que se ha curado gracias a estas máquinas

con las máquinas que compramos entre todos y todas los vascos pagando nuestros impuestos eso es de primero lo que no puede ser es que digamos esas cosas tan gratuitamente y señora rojo que es compatible pagar impuesto y hacer donaciones acaso he dicho yo lo contrario no señora rojo no he dicho lo contrario yo he dicho que hay que pagar impuestos y el que quiera hacer donaciones que las haga

que no quieren escuchar lo que algunos décimos porque es mucho más fácil ir al discurso de estos son los malos de la película y yo no he dicho eso ni siquiera le he dicho a usted que sea mala porque yo estoy

de que usted cree en la sanidad pública universal pagada por impuestos lo sé

su compromiso con la sanidad pública porque no lo voy a hacer pero lo que no puede hacer es poner en duda mi compromiso con la sanidad pública que cumplen sus obligaciones fiscales claro que sí

cada uno define cuáles son esas obligaciones fiscales y ustedes definieron una vez unas obligaciones fiscales y luego se juntaron la derecha para hacerles un favor a aquellos que tenían más patrimonio señor orbegozo que desviamos el debate que si estamos hablando de financiación de servicios públicos estamos hablando de impuestos o es que los servicios públicos

no señores se financian con impuestos vamos a ser serios y no me vengan con que la unidad el trabajar contra el cáncer y demás si eso no lo ha puesto nadie en duda yo no lo he puesto en duda en ningún momento en mi primera frase lo he dicho

a nuestros pacientes en la comunidad autónoma vasca eso es lo primero que he dicho yo pero ustedes no quieren escuchar eso ustedes quieren escuchar

que esta portavoz no ha dicho yo no he dicho en ningún momento que no recibamos una donación ni he dicho que no recibamos la donación del señor

ortega pero lo que he dicho es de verdad era necesario una foto con

de verdad era necesaria esa campaña mediática de una donación concreta se va a hacer ese tipo de campaña con todas las donaciones que recibe la administración pública de cada uno de los ciudadanos de este país pues espero que no porque eso no es serio

sabiendo que existe la ley de patrimonio claro que lo sé pero se trata de poner orden

sino porque estén estipuladas en un documento se trata porque hay que saber qué tipo de donaciones recibimos para qué las recibimos y para eso existe también
un montón de gente que se dedica a la ética empresarial un montón de gente que está estudiando sobre la responsabilidad social amaitu mesedez bukatzera noa

jamás he dicho y jamás diré porque yo he dicho que

a poner en un altar a alguien por el simple hecho de donar hay un trecho

de la foto al señor amancio ortega ha sido usted porque el problema dónde está en la foto del señor amancio ortega en la donación en para qué utilizamos la donación

mire yo creo que aquí por supuesto hay que pagar impuestos

tiene que cubrir las necesidades de todos los ciudadanos en euskadi en madrid en cataluña y en donde sea

para que todo lo que supone lo público lo cubran los impuestos de los ciudadanos en este caso los vascos muy bien cuánto es esa suficiencia financiera y para qué

porque usted sabe perfectamente que el cien por ciento de los impuestos en este caso de los vascos no puede cubrir el cien por ciento de las necesidades de los vascos

lo que ustedes no son capaces de sostener si un día llegan a gobernar en el país vasco señora pinedo porque usted lo sabe igual que yo y eso es manipular

tampoco agradezco que usted crea que yo tampoco lo soy y ya sé que usted no pone en cuestión el sistema público de salud faltaría más igual que no lo hago yo pero ustedes aquí están mezclando las cosas

un sí pero no es un sí nos parecen bien las donaciones pero y usted dice yo no he hablado de fraude porque no hablo de desconfianza y ha terminado su intervención diciendo pero hay que saber

desconfía usted sí o no desconfía usted sí o no y luego

y ustedes tienen en esto temas de los presupuestos y de determinadas cosas

creyendo que de repetir y de repetir las cosas son verdad

subido las empresas con mayores beneficios pagan más ahora que lo que pagaban antes de la modificación y usted lo sabe igual que yo entonces no vengan aquí a contarnos una película que es mentira

ya para mí usted cuando hablamos de estos temas de salud para mí era como el referente porque usted era el profesional de la salud

en el sistema público de salud y además nos cuenta siempre que puede y me parece bien

usted no puede decir que la tecnología la investigación

no está íntimamente relacionada con los resultados de mejoría es que no puede decir eso

ni nada que ver pero habrá que reconocer que si llega una donación de diecisiete millónes de euros y gracias a esa partida presupuestaria concreta se puede adquirir en este caso osakidetza un tipo de maquinaria vinculada al tema oncológico habrá que decirle a los ciudadanos

a la aceptación y la buena aplicación porque las máquinas no curan curan los profesionales la investigación el apoyo y las aportaciones pero es que ustedes quieren decir que les parece bien pero que a la hora de votar que les parece mal y para justificar el no

como si los demás quisiéramos pagar en este caso la sanidad pública pues no sé cómo y verdaderamente me parece injusto luego por concluir en este caso que es lo que nos ha traído el señor barrio porque veníamos a hablar

no hay alusión fiscal qué ley se ha incumplido se ha incumplido alguna ley que podamos denunciar o que ustedes pueden denunciar

eso una dos usted sabe igual que yo como le he dicho que no hay cobertura a cien por ciento de lo público no hay usted habla de suficiencia dígame cuánto cómo y para qué

los presupuestos gastos e ingresos y usted sabe que eso no es cierto y que no se puede hacer y si no

y luego dónde está esa propuesta fiscal de eh bildu

porque ustedes parece que tienen la respuesta a todo pero el voto siempre es el mismo y estamos aquí hablando de una donación concreta que acaba mejorando

política y es que me parece le diría hasta obsceno poner en cuestión las donaciones

y solo nos afecta a nosotros y como le he dicho en todas las comunidades autónomas en unas en las que hay ideologías muy cercanas a ustedes y desde luego muy cerca del señor uria como por ejemplo valencia

se aceptan se reconocen y encima y desde luego yo no resumo diecisiete millónes de euros

porque eso sería hacer política con titulares de periódico y de eso no estamos hablando estamos hablando de dos mil quinientos pacientes afectados de una maquinaria

y de diecisiete millónes de euros sin olvidar que el treinta y tres por ciento aprobado porque ustedes hemos conseguido prorrogar forman parte del presupuesto de salud

por lo tanto seamos serios e intentemos aceptar lo que nos viene de fuera teniendo en cuenta

pagar el cien por ciento porque usted y yo sabemos que eso no es posible
y les están vendiendo a los ciudadanos lo que no son capaces de sostener con el presupuesto en la mano eskerrik asko

despistatuta nengoen me ha costado enterarme de cuál era el objeto

que se resume a eso el objeto del lehendakari

cuál es el problema que saca una foto con amancio ortega como si se la saca una foto con cualquier de las asociaciones

de bien nacido es ser agradecido eta arazoa argazki bat ateratzea

que se curen con esas máquinas a esas personas nahiago dut horren inguruan

izaten el señor uria hablaba de un discurso sencillo

pues escúchese a sí mismo señor uria es que va dando lecciones de paternalismo usted no puede pretender hablar en boca de todo el mundo hablando de los intereses de los pacientes de las tecnológicas de las farmacéuticas no no céntrese en el debate hablaba de que los países con menor presión fiscal son los países en los que más donaciones se hacen no lo sé ya le preguntado de dónde saca esa fuente me ha dicho de la ocde bueno ya lo comprobaremos

el país en el que mayor es el gasto sanitario que no quiere decir

estados unidos estados unidos ve usted la incongruencia que existe en el debate

el mayor gasto en sanidad es en estado unidos y en cambio los resultados en salud

por qué hemos perdido la oportunidad hoy de hablar de resultados en salud ponga como ejemplo también otro estudio de la ocde que se ha publicado en la ocde en que se ha tenido en cuenta

y lo que dice sobre el sistema sanitario en este caso el servicio público de euskadi

datos contrastados pues ese es el debate que nos interesaría de verdad hoy

la labor de los demás reconocer que existe una planificación una planificación para obtener los mejores resultados de salud también en oncología y eso es lo que hemos querido reconocer nosotros en nuestra enmienda transaccional y que finalmente es lo que se va a aprobar eskerrik asko

berdinak dira año dos mil doce en palabras del propio lehendakari nuestro compromiso es poner en marcha un plan de empleo juvenil vamos a poner todos los medios en la formación para el empleo en activar contratos en prácticas y contratos de formación fomentar autoempleo

esa primera oportunidad para acceder a un empleo año dos mil diecinueve sin embargo antes de ayer mismo este gobierno presentó

ver cómo una de ellas está centrada en la juventud en el empleo en la emancipación la brecha generacional por lo tanto el gobierno la sitúa como

dice que es un reto de país la juventud dice que es una cuestión estratégica pero sin embargo hace lo mismo que hasta ahora no hay más que leer

y su plan operativo o la evaluación de los resultados del año dos mil dieciocho del programa marco de empleo

alguna en el plan operativo de actuación para este ejercicio dos mil diecinueve

sin recoger un solo indicador cualitativo y se sigue sin establecer criterios mínimamente objetivables para evaluar la calidad de los puestos de los empleos generados por cierto desoyendo una vez más lo aprobado en este mismo parlamento

nolabait porque nos preocupa mucho que la tasa de desempleo juvenil siga siendo el doble que la media europea nos preocupa que el salario medio de los jóvenes entre dieciséis y veintinueve años

en dos mil diecisiete se formalizara un solo contrato en dos mil dieciocho seis contratos

que va por el mismo camino nos preocupa mucho que el alquiler medio en euskadi esté situado en una media de novecientos cuarenta y cuatro euros según datos del observatorio de la juventud y que sin embargo el programa

en setecientos cincuenta euros el límite para recibir dicha ayuda nos preocupa mucho también que la última década el presupuesto de vivienda en euskadi haya disminuido un treinta y cuatro por ciento mientras

en los precios de alquiler nos preocupa que nuestros y nuestras jóvenes estén a la cola de europa en la edad de emancipación nos preocupa

autocomplaciente del gobierno la nula reacción a la vista de los resultados y datos y la falta de voluntad o

los problemas estructurales que padece la juventud en este país y esto queda hoy nuevamente en evidencia con la enmienda transaccional que han presentado los grupos que

como objetivo porque tal y como canta la tremenda jauría en un potente tema que comienza con el latido del corazón en un sistema contra la vida

amaitzen joateko para ir terminando y aprovechando la presencia de representantes de la juventud yo no soy muy partidario de dar consejos la misma de como suele decirse hablar desde la voz de la experiencia que además

ya que como decía el propio che la juventud tiene que crear una juventud que no crea es una anomalía realmente así que

de personas que han dedicado toda su vida a crear un mundo con una humanidad mejor y por eso

histórico discurso del expresidente de uruguay pepe múgica en su alocución ante una multitud de jóvenes

de ocho de diciembre de dos mil catorce en guayaquil y dijo pepe múgica ante dicha multitud de jóvenes

si sos joven tienes que saber esto la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar más vida entonces lucha por vivirla por darle contenido a la vida la diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú

puedes darle contenido o no o puedes enajenar tu vida y que te la compre el mercado

y peleaste por una esperanza e intentaste trasmitirle a los que quedan quede un pequeño aliento rodando en las colinas en los mares un pálido recuerdo que vale más que un monumento que un libro que un himno que una poesía

nada vale más que la vida luchen por la felicidad y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejar que te la roben

evaluar el impacto de todas las políticas públicas realizadas por las instituciones de la comunidad autónoma de euskadi en las personas jóvenes por lo tanto

no entre ninguna ley ni nada parecido sin una evaluación de su impacto en las personas jóvenes porque eso es lo que aprobó este mismo parlamento el pasado dos de mayo estaba leyendo ya el señor estarrona también ha hecho referencia durante esta semana las directrices económicas del presupuesto que presentó el martes el gobierno vasco

dividido en cuatro apartados empleo emancipación brecha generacional y pobreza infantil que la verdad señora artolazabal

que igual me puede explicar qué tiene que ver la pobreza infantil con la juventud porque realmente yo no lo tengo muy claro pero al lío

lehen aukera las prácticas precarias subvencionadas con dinero público

programa interesante para la demagogia y los grandes titulares pero con resultados pésimos

mucho más útil menos titular y por ejemplo ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible y tercero contrato relevo el cual dijo claramente el viceconsejero muro que había fracasado ya que solo treinta personas de las cien que se esperaban se acogieron al mismo

más adelante podrá decírmelo incluso el señor azpiazu en las reuniones que vayamos a tener de cara a los presupuestos pero va a ser este el panorama

y seguirán ustedes renunciando a legislar el presente poniendo las bases para un futuro digno para las personas jóvenes pero desde luego

mal empieza la nueva década para la juventud vasca una década para los jóvenes y para las jóvenes de euskadi parece que arrastra lo peor de la anterior el desempleo la temporalidad la parcialidad involuntaria o los salarios basura

de personas jóvenes de euskadi que cobran por debajo del umbral de la pobreza

le parece a usted normal que un joven una persona joven por el hecho de ser joven trabaje ocho horas al día y cobre por debajo del umbral de la pobreza de euskadi

cuando empecé la carrera en sarriko en dos mil ocho hace ya once años justo el año en el que quebró

se nos decía e incluso se nos enseñaba en la universidad que había golpeado una crisis muy muy dura y que todavía

durante los próximos años en aquel entonces además bueno ser mileurista estaba visto era una basura casi ser mileurista y en la actualidad parece que casi es

y es que vemos que casi doce años después vemos que lo que se nos decía en la universidad en aquel entonces sobre la crisis que no era verdad que no eran unos años sino que se había configurado un modelo de empleo juvenil precario que no se limitaba al periodo de crisis e indagando un poco más

influyen claramente los factores estructurales que hacen de la precariedad un elemento central del mercado laboral pero también cómo están los factores institucionales es decir que influye

y por eso necesitamos poner la mirada joven poner la mirada de una generación entera

y decía anteriormente que un plan de choque no es la solución para nosotros

pero entendemos que puede dar respuesta a muchas vidas y proyectos de personas jóvenes en la actualidad sin embargo creemos que el horizonte de las instituciones públicas vascas no debe ser el de parchear sino el de legislar para un futuro que realmente merezca la pena ser vivido por las personas jóvenes no como el presente actual que nos condena a las más absoluta precariedad día tras día y me da pena pensar

como en euskadi se hace realidad esa viñeta del roto en la que empresarios sin escrúpulos decían necesitamos jóvenes bien preparados y con ganas de trabajar

y creo que este gobierno no puede permitir que esto suceda y menos aún que lo financie con dinero público de todos y de todas las contribuyentes en euskadi necesitamos

que garantice que las personas jóvenes tenemos unas condiciones dignas para afrontar con ilusión y con dignidad nuestro futuro y ustedes las personas que gobiernan

porque de verdad les digo que están quemando a una generación entera y no nos merecemos esto porque somos la generación más preparada que ha habido en euskadi y nos habéis condenado al sufrimiento y tienen ustedes la oportunidad de cambiar el rumbo para las generaciones futuras pero para eso necesitan

a todos y a todas he bajado conmigo no suelo al atril más que la intervención pero he bajado conmigo una serie de documentos que yo creo que resultan de interés que se conozcan su existencia el primero se publicó en el boletín oficial del estado

el segundo nos lo presentaron en la comisión de empleo hace escasos tres meses y a primeros de años se presentaba también la estrategia contra la brecha salarial

de que ningún plan se tiene o que ninguna estrategia se sigue

de empleo por la que se publicaba un acuerdo del consejo de ministros del siete de diciembre

el plan de choque de empleo joven dos mil diecinueve dos mil veintiuno en el que también participa la dirección de empleo del gobierno vasco es un plan de choque dirigido a los jóvenes

a las personas jóvenes de su propio proceso de inserción laboral y de cualificación y es un plan que desarrolla también la formación específica en igualdad de oportunidades entre mujeres

es un plan que tiene seis ejes estratégicos trece objetivos estratégicos

medidas un plan para el que se establece una dotación presupuestaria para el ejercicio dos mil diecinueve de seiscientos setenta millónes de euros y comienza así

para que pusiéramos en marcha un plan de choque contra la precariedad juvenil que a pesar del nombre no debe de ser muy urgente porque ustedes han dejado este asunto en cola pues unos cuantos meses es una iniciativa que a pesar de lo que le digo

solamente marca una medida concreta solo hay una medida concreta en su iniciativa y es poner en marcha una línea de subvenciones para apoyar la realización de contratos indefinidos entre jóvenes a jornada completa hasta aquí la concreción el resto filosofía

líneas actualmente en marcha de subvenciones para financiar la contratación indefinida de los jóvenes el programa lehen aukera que ustedes demonizan pues subvencionan los contratos indefinidos con jóvenes

euros ahora bien si yo sigo leyendo yo creo no sé si me despiste en algún momento de su intervención pero el eslogan suyo

su iniciativa la de origen y la pactada me habla de algo que a mí me suena mucho que ustedes han venido repitiendo y vienen repitiendo y es el famoso tema de la garantía de los mil doscientos euros de

a lo que usted sabe que los socialistas le contestábamos siempre con los mismos argumentos y que hoy no me voy a sustraer de ellos se los pienso repetir ayer me advertía usted por correo electrónico hombre ya sé que hay cuestiones

no podemos entrar con ustedes en este asunto y el primero es porque para garantizar un salario mínimo señor estarrona ya el gobierno socialista que lidera pedro sánchez ha aprobado hace unos meses que nadie pueda cobrar en el dos mil diecinueve menos de doce mil seiscientos euros al año los novecientos euros del salario mínimo interprofesional es decir la primera herramienta que tenemos para fijar un salario mínimo es precisamente ese

la conocen perfectamente aunque solo sea por la cantidad de veces que yo se la repito desde esta tribuna

mínimo la tienen los convenios colectivos o se realiza a través de los convenios colectivos y saben también que no somos nosotros los parlamentarios sino los agentes sociales

pues deben negociar y acordar las diferentes condiciones laborales en las que se tienen que desarrollar los contratos de trabajo en euskadi en españa y donde toque y en ello están les recuerdo se lo he recordado quinto acuerdo estatal sobre negociación colectiva establecimiento progresivo para el dos mil veinte de un salario no inferior a catorce mil euros al año yo se lo dije a ustedes hace unos meses y alguno ha terminado de esa forma que juegan a una política de titulares

que están más centrados en eso que en el desarrollo y en el apoyo real a medidas concretas para mejorar la situación de las y los trabajadores en euskal herria

y está muy bien también decir como esta votación no me interesa que no ha salido como yo quiero

queda radicada cualquiera de las propuestas que se quieren

en la que no tenían que pedirlo desde una tribuna porque son una oposición con intención y con compromiso sino que allí eran gobierno

sin intención y sin compromiso y también les quiero recordar y usted ya lo sabe que entre la fecha en que usted presentó esta iniciativa del famoso plan de choque y el debate que estamos teniendo hoy

plan operativo de actuación dos mil diecinueve dirigido especialmente

y tenemos además un plan con actuaciones operativos ustedes hablan de plan de choque nosotros hablamos de plan operativo igual la terminología también

las cuestiones este plan y ustedes lo saben está relacionado entre otros con el plan estratégico de empleo con el plan director de vivienda con el plan operativo por reducir la brecha salarial en euskadi

en la consecución de ese objetivo que ustedes también dicen perseguir que es la emancipación de la juventud la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida

el plan lo saben ustedes no lo dicen pero facilita los datos del último informe sobre la situación de la juventud en euskadi que ha publicado el observatorio vasco de la juventud que no son coincidentes en nada con lo que usted pone en su iniciativa

de datos porque todas y todos podemos entrar en la página web del observatorio de la vivienda y nos podemos leer perfectamente el diagnóstico sacar las conclusiones yo no soy tan sumamente dramática ni pesimista yo creo que además la juventud suele ser por índole optimista es en la época en la vida en la que tienes más ganas de pelea y más fuerzas para hacerlo

no llevan a ningún lado les voy a destacar solamente alguno de los datos en educación y en formación lo que dice es que el abandono escolar prematuro

las de grado universitario un setenta y cuatro coma tres que el empleo ha descendido la tasa de paro juvenil cerrando el dos mil dieciocho con una tasa del dieciséis coma uno por cierto es inferior la tasa de mujeres que la de hombres la temporalidad es alta cierto

y en el resto de colectivos de trabajadores y especialmente en mujeres tanto jóvenes como no tan jóvenes el salario medio neto de una persona joven ocupada en euskadi está en mil noventa y tres euros no sé si eso es el umbral de la pobreza o no pero son mil noventa y tres los datos hacen constar en el informe ya les digo un plan que nosotros llamamos operativo ustedes prefieren otro tipo de calificativos no tenemos una sola línea de subvenciones en este plan que les hemos presentado o que se les ha presentado por el gobierno sino que hay doscientos doce actuaciones unas subvenciones otras

es un presupuesto que no tiene veinte millónes de euros tiene doscientos cincuenta y dos millónes de euros en concreto en el área de empleo un total de setenta y uno actuaciones y sesenta y siete millónes de euros desde luego no con sus votos

que no priorizábamos gasto ni incrementábamos gasto ni introducíamos gasto para el dos mil diecinueve estamos mejor saliendo a hablar y no comprometiéndonos

líneas de subvenciones a la contratación incluida esa que ustedes ahora quiere de indefinida que ya las tenemos los contratos relevo las becas de transito del mundo educativo al laboral

de inserción de emprendimiento es un plan que parte de los datos del dos mil dieciocho y que propone nuevas actuaciones o la revisión de algunos de los programas o acciones existentes evaluación

y nos gusta mejorar pero es que además pretender desconocer y se lo ha dicho que el gobierno vasco ha presentado también el plan operativo para reducir la brecha salarial dos mil diecinueve dos mil veinte con tres retos que es eliminar la discriminación salarial

sesenta medidas doscientos ochenta y tres millónes no es que haya una línea de trabajo para actuar con la brecha salarial sino que hay sesenta

un plan de choque con una medida concreta sino que tenemos por lo menos tres planes interrelacionados con un montón de medidas y con presupuesto asignado es un plan multidepartamental no se soluciona la situación de la juventud ni de la población de euskadi con una sola medida

tenemos muy claro yo no sé pero me da la sensación de que nos sería mucho más útil como ha dicho el señor bollain estar menos a los titulares y querernos comprometer un poquito más de todas formas ahora empezaremos a la vuelta del verano con un documento bastante importante para eso de demostrar lo que realmente queremos decir aquí y queremos trasladar a los jóvenes se llama presupuesto dos mil veinte

de decir que no están por no ser útiles y que están por comprometerse
con la juventud y con el resto de ciudadanos de este país gracias eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak gurrutxaga

duela gutxi aurten sara de la rica luís miller y lucía gorjónek

horrek ere bai kezkatzen gaitu y después de hacer un análisis sobre esta situación de los jóvenes vascos en este informe también hacen un estudio sobre cuáles son las experiencias internacionales sobre políticas públicas de empleo y hacen unas propuestas concretas para euskadi

un programa experimental también nos piden el observatorio de salidas laborales por especialización formativa

y en tercer lugar la formación grupal en el primer contacto con lanbide al acabar los estudios

que se llama lanbide sarea y que esperamos que pronto se pueda poner en marcha beraz bai datuek arduratzen gaituzte eta ez gara konformatzen

consejero señora artolazabal

en otras presentaciones de planes y de estrategias de empleo sobre la situación del empleo de los jóvenes

que cada uno puede coger un dato y hacer demagogia de él y defender cualquier postura yo le voy a dar

y he buscado uno que creo que es ni el mejor ni el peor y es el resultado de la evolución de las políticas de empleos respecto de los jóvenes que tiene este gobierno

esa fuente es el dato de empleo que usted se encontró entre los menores de veinticinco años y que usted ha dejado en los dos primeros años de legislatura

diecinueve coma seis por ciento de los jóvenes que querían buscar un empleo que querían empezar a trabajar

uno de cada cinco no podía trabajar cuando estaba intentando hacerlo dos años después en el diecisiete y en el dieciocho ya gobernaban ustedes habían puesto

los planes y estrategias de empleo para acabar con la precariedad del empleo juvenil y ese dato había subido del diecinueve coma seis al veinticuatro coma dos cinco puntos prácticamente

cinco jóvenes que quería trabajar y no lo conseguía ya estamos en uno de cada cuatro jóvenes que quiere y no lo conseguía son datos del año completo

dejando de lado que la evolución de la población encima en este marco

dentro de esa edad unos porque se han marchado y otros porque la población el crecimiento vegetativo es negativo cada vez tenemos menos jóvenes

muchísimo más que yo de estas cosas si dejáramos constante la variable de la población pues en lugar de ir a uno de cada cuatro jóvenes que quieren trabajar pues nos iremos prácticamente al treinta por ciento a uno de cada tres

lo importante es la evolución que ha sido negativa que ha ido mal y aquí hace un momentito nos decían que las cosas iban bien y que tenemos instrumentos y que funcionan

porque hay en marcha muchas estrategias muchos planes que lo que están dando realmente es un resultado

ese paro juvenil entre lo que es el sector de la población femenina

si comparamos esos datos de evolución de empleo de los jóvenes en otras franjas de empleo

al menos al espectro de la población al que se dirigen las políticas

yo lo que quiero poner de manifiesto señora artolazabal es que efectivamente la evolución

de las políticas puestas en marcha por el gobierno de las personas en este aspecto concreto en otros habrá que felicitarle en este aspecto concreto es malo el resultado es negativo es el gobierno de las personas mayores desde luego no es el gobierno de las personas jóvenes

y eso tiene un impacto en nuestra actividad económica y en nuestra realidad social brutal porque son nuestros jóvenes los que se marchan

facilidad para hacer un desarrollo de vida en nuestra tierra se tienen que marchar fuera se van y esa riqueza esa formación que han adquirido

se van de aquí y eso es lo que pierde la sociedad vasca por eso yo no estoy de acuerdo en absoluto con las políticas de empleo que nos proponen desde eh bildu y desde elkarrekin podemos yo no comparto

las recetas que ponen para los males que creo que son evidentes y patentes y que usted misma conoce

no comparto ese tipo de recetas pero sí comparto que hay que hacer una llamada de atención y por eso voy a solicitar que esta iniciativa se vote por puntos porque creo que hay una parte que sí que es importante que es

y que haga un toque de atención a esa política que están realizando ustedes y que los portavoces de los grupos y en este caso más que sustentare soportan al gobierno

que estamos muy bien y que tenemos muchos instrumentos y que las cosas van fenomenal cuando todos sabemos que no es real

porque en ese aspecto su política es un poquito fracaso

en el de la situación laboral de nuestros jóvenes la política del gobierno vasco ha sido

estábamos hablando solamente de aquellos que querían trabajar imagínese si entramos a analizar qué tipos de contratos se encuentran cuando es contrato a tiempo parcial cuando lo que quieren es a jornada completa

enfrentamos a las remuneraciones que perciben por esos trabajos respecto

en esa situación bueno no le quiero contar las críticas que le podrían llover yo me quiero quedar

es muy simple es muy objetivo y además es veraz la situación la evolución ha ido a peor

deseando encontrar un trabajo en otras comunidades autónomas y en europa y que además estamos doblando el porcentaje

desempleo a nivel bruto con lo cual nos estamos saliendo también de la evolución que tienen el resto de los países de nuestro entorno en europa por eso solicitaré si es que los grupos que han firmado la transacción nos lo admiten la votación por puntos porque creo que es necesario poner píe en pared y que el gobierno despierte
y empiece a pensar realmente en lo que es nuestro futuro que es el trabajo de nuestros jóvenes muchas gracias eskerrik asko

no comparto estilo no es mi estilo el de ridiculizar los planteamientos que hacemos otras agrupaciones políticas otros grupos parlamentarios

titulares incluso diciendo que es una carta a los reyes magos una propuesta que está bastante bien detallada y que además el gobierno tuvo encima de la mesa de las cuestiones aquí planteadas en una negociación presupuestaria seria que llevamos en el anterior ejercicio presupuestario por lo tanto carta a los reyes magos ninguna y realismo todo y

hablaba la señora castelo de la urgencia que teníamos habiéndola no presentado en enero si la hubiesemos presentado antes de las citas electorales seguramente nos hubieran tildado de electoralismo porque ustedes únicamente

no suelen ir al fondo de la cuestión porque tienen muchas contradicciones en este gobierno que ustedes comparten con el partido nacionalista vasco porque muchas de las cuestiones que ustedes plantean en madrid

de novecientos euros es muy sencillo entender por qué por qué nosotros aquí lo que planteamos y no nosotros también los sindicatos y otros movimientos y agentes sociales plantean los mil doscientos euros estatu espainolean

sabemos que no tenemos competencia para establecer un smi pero en aquellas políticas en aquellos programas y aquellas medidas que este gobierno pone en marcha impulsa sí que puede establecer

al mercado laboral y decía que iba a ser difícil el acuerdo porque ya le había adelantado que no iba a renunciar

pero no renuncio a mis principios ni al sentido común tampoco tal y como le he planteado por eso solicitamos

y porque si en madrid se ha puesto en marcha un plan de choque no es posible poner aquí un plan de choque

aquí ustedes que tienen el departamento de vivienda en sus manos no son capaces de ponerlo y sin embargo el bataz besteko de alquiler son novecientos cuarenta y cuatro euros y directamente con el plan gaztelagun están dejando fuera a todos los jóvenes y las jóvenes de donostia donde el alquiler está ya en mil doscientos euros o sea en mil cuatrocientos euros y en gipuzkoa

y que han sido introducidos y mejorados en el plan estratégico de empleo en el plan operativo de actuación de

volvemos a ver que no hay indicadores cualitativos que como usted dice señora gurrutxaga

qué es lo que este gobierno debería hacer qué políticas debería implementar para mejorar la calidad de empleo que es la asignatura pendiente porque el programa estrella que es lehen aukera si vemos en este

solamente los únicos indicadores que hay establecidos para ver

en las ayudas y esto nos parece que además se está llevando a cabo un incumplimiento constante y continuo porque aquí

aprobadas iniciativas que van en el sentido de establecer de una vez por todas en estos programas

en estos planes de gobierno indicadores cualitativos porque si no y se ponía como ejemplo que en los contratos indefinidos con lehen aukera

superior a los contratos parciales pero bueno yo desde un punto de vista de empresario

para la empresa aparte de la creación de empleo y otra serie de objetivos decir si tengo la opción de una subvención contrato en prácticas al menos de doce meses de ser subvencionado con cinco mil cuarenta euros y sin embargo por un indefinido

euros más por este gobierno evidentemente creo que la diferencia subvencionable

importante como para realmente impulsar los contratos indefinidos

porque ejecutar un treinta por ciento de un plan que es el buque insignia del gobierno en cuanto a empleo juvenil pues

cómo se atreve señor ruiz de arbulo a decir que la situación ha ido a peor para los jóvenes si bueno ya ha dicho la representante del partido nacionalista vasco ya dice el gobierno que se está mejorando que hay que seguir mejorando más pero que el gobierno está en ello baina gauza da

baina si se sigue haciendo lo mismo las cosas no van a cambiar nunca si llevamos seis siete años haciendo

y el gobierno está metido en esto la señora artolazabal no hace absolutamente nada para que cambie lo referente a la situación de los jóvenes en euskadi la señora artolazabal y el viceconsejero muro que no están haciendo absolutamente nada

los años anteriores repite en el presupuesto repiten las cantidades que no se ejecutan en años anteriores es un auténtico despropósito lo que está pasando con este gobierno respecto

política de titulares decía bueno que diga eso una persona que sustenta o una persona que representa a un partido que sustenta al gobierno en marketing en europa tiene tela lo segundo que decía usted

una apreciación a lo que decía el señor estarrona en euskadi

el alquiler medio está ya en los mil cuarenta y siete euros

tener algo de ocio esas cosas a los jóvenes no nos da con cincuenta euros entre el alquiler medio y el sueldo medio de los jóvenes y

tenemos que dar las gracias a este gobierno vasco por ser mileuristas yo creo que no

con planes a peso parece que ustedes miden los planes a peso pero por qué se van obtener con planes a peso mientras hacen lo mismo mejores resultados

en vez de venir con planes a peso podía usted haber protestado su partido haber protestado en el consejo de gobierno cuando se amparó el cierre de la naval y la industria se va desplomando año a año en euskadi ya por debajo del veinticinco por ciento del pib y están ustedes condenado a los jóvenes que vayamos

eso es lo que realmente nos condena a los jóvenes y en cuarto lugar claro está

en estos debates que vienen de ahora a diciembre va a entrar los presupuestos en absolutamente

no es aceptar pulpo como animal de compañía por treinta millónes de euros porque ustedes

y nuestra utilidad para la sociedad de este país no es mercadear a la baja por treinta millónes de euros a ver que podemos rascar a este gobierno nuestra utilidad no esa nuestra utilidad está

la vida de toda la ciudadanía de euskadi y sabe qué propusimos nosotros para esos

no se aprobaron nosotros propusimos un plan de empleo por valor de ciento cincuenta millónes de euros propusimos el rescate público de la naval

para que no se explote a las personas jóvenes de euskadi propusimos políticas de vivienda también dirigidas a las personas jóvenes propusimos que la renta de garantía de ingresos

y veintitrés años cosa que este gobierno no quiere cosa que el departamento de la señora artolazabal no quiere hacerlo propusimos también aumentar en treinta millónes de euros para ampliar y mejorar

de la upv propusimos también un plan retorno de seis millónes de euros con medidas para personas jóvenes

oportunidades en este país eso es lo que es hacer una política

planes a peso medir los planes a peso cuando no se está haciendo absolutamente nada que no se haya hecho en años anteriores y que se haya visto que no ha funcionado porque la señora artolazabal será economista como decía el señor ruiz de arbulo pero de audiovisuales poco porque si escucha ni oye a la oposición

hemos pedido hemos pedido hemos pedido qué han conseguido qué han conseguido nada en qué consiste la utilidad para qué están ustedes aquí

sentarse cómodamente detrás de un escaño y no comprometerse en el compromiso en el alcance de acuerdos con formaciones políticas diferentes

renunciar a principios nosotros no renunciamos a principios pero sí entendemos que hay que acercar posturas para conseguir que se pongan en marcha medidas

de las personas que vivimos en este país y yo no ridiculizo ninguna propuesta ni vengo con propuestas al peso normalmente no suelo bajar con nada pero claro ustedes pretenden decirme con esta hoja milagrosa

en fin es que si tenemos que ir contraponiendo las historias pues es un poco lo que hay yo no quiero ridiculizar lo que le digo

solo hay una medida concreta solo hay una concreta luego hay filosofía diciendo que tenemos que poner también en marcha medidas que favorezcan la contratación de mujeres que tenemos que poner medidas que favorezcan la eliminación de la brecha salarial pero en eso estamos todos en esa filosofía lo hubiesemos firmado la señora maialen gurrutxaga y yo claro que ahí estamos todos solo tenía usted esa medida concreta

la formación de elkarrekin podemos pero ya le ha dicho mire el plan de choque no es una herramienta aun así le voy a apoyar

lo que hace subvencionar la contratación indefinida además de otras pero también la indefinida con hasta diez mil euros si es indefinida y es en caso de mujeres pues esa no sirve pero si me están proponiendo una línea de subvenciones

que reciba dinero por contratar y el señor bollain en su exposición me dice es que no tenemos que poner dinero público en esas empresas vamos a ver a ver si nos aclaramos porque están ustedes siendo contradictorios están ustedes siendo contradictorios y

está muy bien pedir las cosas y está muy bien luego parapetarse en el escaño

de ahora en adelante lo del presupuesto mire vale para antes y para después y vale para más adelante por lo que han hecho ustedes ustedes desde que empezaron y ustedes que no son capaces de saltar ese vértigo que les da llegar a acuerdos con otras formaciones algún día deberían de hacerlo y deberían de

no le voy a intentar explicar el por qué porque ya lo he hecho en esta tribuna usted me ha escuchado y además sabe que es reiterativo cuando yo bajo aquí lo que significa para nosotros el instrumento del salario mínimo interprofesional para todo el mundo

igual ya se lo dije en su momento gallegos extremeños andaluces madrileños o vascos nos da igual

en otro momento con otro barniz y con otra pelea no es la nuestra y ahí no nos van a encontrar y luego son contradictorios porque me dicen el programa

que se ha puesto en marcha para los jóvenes para ayudarles a su emancipación y que está teniendo una buena acogida

es que está limitado a setecientos noventa y los alquileres medios son más pero en la siguiente intervención me ha dicho que no somos valientes para poner un precio tope a los alquileres pues aclárese porque si décimos que alquileres hasta setecientos noventa lo que queremos es forzar a que no se paguen alquileres por encima de esa cantidad

se ha tenido hace no demasiados meses y ahí en esa necesidad de acuerdos y en esa retirada de otros

a retaguardia pues ha quedado como ha quedado bueno las cosas siempre se pueden retomar pero sí que es cierto que nosotros no somos complacientes pero creemos que el gobierno sí está alineado en ese objetivo que ustedes dicen perseguir

de los jóvenes y del resto de trabajadores en este país en ese sentido nosotros no podemos apoyar

y vamos a mantener nuestra enmienda y nos resulta curioso que el partido popular

la presidenta del consejo vasco de la juventud y ella hizo una frase que hoy ha repetido también el señor bollain y es que la situación ha mejorado con respecto al dos mil quince y no lo dice ni el ine ni el eustat sino el representante de los jóvenes de y si nos tendríamos que poner a preguntar por qué de la precariedad laboral no solo en el colectivo de los jóvenes sino en el conjunto del mercado laboral igual alguno tendría que hacer reflexión mirar dónde tenemos la causalidad o el problema de la causalidad de los contratos temporales

reforma laboral y si usted se acuerda quién la hizo eskerrik asko castelo anderea

eskerrik asko presidente andrea bueno en ningún momento he querido ridiculizar a nadie creo que todas las propuestas que se traen aquí son debatibles y creo que son lícitas y legítimas y no he querido hacer eso ahora sí creo que no son realistas y eso es lo que he querido subrayar y lo que creo es que se pueden pedir muchas cosas pero luego realizar hay que ver lo que se puede

aurkitzen garen luego no sé si hablo muy rápido o no me expreso bien

todo vaya bien todo lo contrario he repetido en varias ocasiones que estamos ante una juventud

que todo eso tiene que cambiar y que creo que hay mucho trabajo por hacer pero también creo que se está haciendo y que hay muchas líneas abiertas en las que podríamos colaborar

gracias señora presidenta reitero la petición a los grupos que han firmado la transacción tanto a eh bildu como a elkarrekin podemos para que nos permitan votar por puntos su enmienda su acuerdo entre ambas

nos gustaría votar que sí a favor de los dos primeros y lógicamente no compartimos los dos segundos porque insisto en que el diagnóstico creemos todos que es negativo casi todos en esta cámara que es negativo pero las soluciones desde luego que proponemos

sus soluciones no son las más válidas no comparto ese salario mínimo de mil doscientos euros para cualquier joven con un contrato indefinido a la situación de que aquellos que tienen más de treinta y uno años no tienen por qué tener esa percepción salarial lo que estaríamos consiguiendo es que esos jóvenes no trabajaran y lo hicieran los de treinta y dos treinta y tres en adelante cubriendo esos puestos de trabajo e impidiendo que se desarrollaran

a los jóvenes lejos de protegerles destruiríamos esas posibilidades de empleo el que haya más o menos cantidades en un plan de choque en los presupuestos generales de la comunidad yo creo que ese es un debate que se va a abrir espero a partir del mes de octubre

efectivamente qué partidas son las importantes les he dicho que no compartía ni las políticas de empleo de eh bildu

que tampoco compartimos evidentemente las del partido socialista que nos dice ahora que la precarización de los jóvenes de los puestos de trabajo de los jóvenes su mala situación en el empleo o las malas condiciones de aquellos que sí tienen empleo es culpa

popular mire señora castelo cuando entra el partido socialista por la puerta del gobierno el empleo sale por la ventana y se tira desde el ático no le voy a dar datos concretos año a año váyase usted y mire la evolución del empleo creando miles y miles

aun así destruyen empleo neto por qué porque se cargan el empleo privado con sus políticas de empleo con sus políticas laborales con sus políticas económicas con sus políticas de relaciones laborales un completo dislate y si no tiempo al tiempo y ya veremos

hace un año y cómo van a ir este año cuando ya tengamos los datos comparativos de este periodo en concreto señora gurrutxaga yo le tiendo la mano efectivamente para poner en marcha

con autocrítica las cosas se han hecho mal que es lo que yo no he oído todavía hace poco repasando el debate de hoy veía las declaraciones de la señora artolazabal que decía que efectivamente se ponía la medalla en nombre de todo el gobierno que se había generado una primera

bastante positivo eso es ver la botella medio llena yo en estas cuestiones prefiero verla medio vacía y me gustaría saber si ustedes señora artolazabal se hacen responsables

de aquí a buscarse la vida en otros sitios donde las políticas parece ser que sí que eran más correctas que es más fácil trabajar que es más fácil ganar más dinero del que nuestros jóvenes tienen la oportunidad en nuestra comunidad por eso queremos apoyar esa parte de la iniciativa para dar un toque de atención al gobierno y que cambien las políticas de empleo dirigidas a

uno y dos y el resto vale ba orduan bozkatuko dugu

muchas gracias señora presidenta buenos días de nuevo miembros del gobierno y compañeros de la cámara

este debate que propongo hoy esta moción esta iniciativa no es nueva isiltasuna mesedez ya ha sido debatida preguntada contestada

en la tesitura de intentar sacar adelante una moción que

las normas hace ya unos cuantos meses preguntábamos a la consejera de seguridad a la señora beltrán de heredia

de trescientos vehículos que parece ser que no cumplían las necesidades

los agentes más cercanos a la seguridad ciudadana porque son los vehículos con los que patrullan las calles vehículos con distintivos con o sin mampara ciento cincuenta con mampara y ciento cincuenta

nos dijo que las quejas eran muy pocas

dando a entender como que carecían de validez o que no tenían ningún tipo de importancia y que la compra había sido satisfactoria porque a ella le llegaban las alabanzas y el agradecimientos de muchos más agentes que aquellos que habían presentado la queja formal a mí me tranquilizó su respuesta porque

y necesitamos que se debata se investigue en el parlamento y se solucione

quizá porque no lo sabía no se lo habían contado desde su departamento o porque decidió ocultarlo

para salvar la posición de la compra de esos vehículos en un expediente sancionador que ya estaba en marcha y que había abierto la inspección de trabajo

no nos dijo nada ridiculizó las quejas dijo que eran fotocopias de un sindicato pero no nos habló algo que yo

que la denuncia era seria y que para defenderse de ella era necesario

de un experto que garantizara la posición que tenía el gobierno ese informe a dedo para defender al gobierno ya dice claramente que la compra de los vehículos no está bien hecha y que esos vehículos pueden ser perjudiciales para los agentes de la ertzaintza trescientos vehículos de dos mil

varios miles de agentes que son los que utilizan esos vehículos a diario

en cinco años y ha tenido que ir la inspección y decir que efectivamente la compra estaba mal hecha yo le interpelé hace poco sobre ese asunto y tampoco tenía toda la información que hoy parece ser que sí que la tengo que es la resolución definitiva de la inspección de

como técnicas tendentes a que esos vehículos que no han cumplido

de los agentes resulta que

financiero no nos permite devolverlos y que sean sustituidos por unos nuevos antes de que acabe ese periodo por lo tanto hay que tomar medidas tan ridículas como aquella que pide a los agentes que paren el vehículo

ni de hombro ni de espalda ni de cuello cosas tan absurdas como esa señora consejera cosas que usted desde un principio nos quiso ocultar y es por eso por lo que hoy después de esa interpelación en la que usted no fue franca

hemos tenido que traer esta iniciativa en la que le exigimos dos cosas bien sencillas que cumpla la ley y esto

exigir cuando lo han pedido otros compañeros de otros grupos que el gobierno cumpla las leyes es que me parece una verdad de perogrullo oiga si no las cumplen habrá que ir a los tribunales o habrá que tomar otro tipo de iniciativas pero después de su comportamiento y de sus respuestas en este asunto

presentaron las denuncias correspondientes y que les han dado la razón me preocupaba que efectivamente usted dentro de los plazos previstos fuera a cumplir con esa petición de la inspección de trabajo

señora beltrán de heredia que tomen las medidas técnicas para reparar en la medida en que sea posible los vehículos para que cumplan con

las obligaciones legales de que sea un lugar habitable para los trabajadores que pasan largas horas de su jornada dentro de ese vehículo y realizan ciento de miles de kilómetros

para evitar que tengan verdaderos problemas de salud que ya que no completamos la plantilla de la ertzaintza ni a tiros porque no conseguimos que pasen los exámenes porque por lo visto no está bien planteados a ver si encima

mal elegidos por algún técnico técnicos que desde luego

completo dislate y la otra más grave desde el punto de vista

señora beltrán de heredia es que la próxima vez que vayan ustedes a realizar otro arrendamiento financiero que no sé si le tocará a usted porque este cumple dentro de dos tres años dos años me parece que es

la elección de los nuevos vehículos por favor que se tenga en cuenta

salud laboral de los trabajadores los delegados de personal en materia de salud laboral cosa que se había incumplido y que le han tenido que tirar las orejas

señora beltrán de heredia si las cosas eran sencillas eran tan claras y eran tan evidentes que hemos llegado a un acuerdo

y le vamos a exigir entre todos que por favor que cumpla la ley lo antes posible

vengan a este parlamento y nos cuenten cómo han cumplido qué bien han hecho las cosas y cómo los coches por fin están como debían estar antes de realizar esa compra que evidentemente no se hizo conforme

pido a elkarrekin podemos y a eh bildu que apoyen esta iniciativa lógicamente para que

técnico creo además con un desenlace

satisfactorio quiero recordar simplemente que

cuando salió a concurso la renovación de los coches

y que esos coches cuando se han puesto en circulación a una determinada

ha generado algún problema bueno esto digamos que es un problema técnico que puede ocurrir

en un servicio de siete mil y pico de agentes

tipos de vehículos por lo tanto también con soluciones coyunturales

y de seguridad laboral de las funciones que tienen encomendadas creo que es un problema

pudiera darse el hecho de que haya venido tantas veces a esta cámara de hecho se ha obrado como corresponde es la autoridad laboral la que tiene que determinar cuando hay un problema

hay que resolver las deficiencias técnicas que se pueden dar en cualquier puesto de trabajo

el informe lo tiene el gobierno el gobierno sabe que tiene que cumplir con lo que se plantea está en disposición de hacerlo estamos en el plazo de hacerlo además porque la inspección da un periodo de tiempo para poder resolverlo y

un poquito excesivo en un pleno de parlamento tener que abordar un problema particular tan concreto como este pero bueno en la medida en que hay una iniciática pues lo hablamos pero en fin creo que tiene poquísimo recorrido está todo planteado

todo el mundo sabe lo que tiene que hacer estamos en plazo se hará y la mejor demostración de que tiene poco recorrido

qué se le va a hacer a un informe que dice la autoridad laboral que hay que

otra cosa no creo que sea el parlamento el lugar donde tengamos que entrar en los aspectos de detalle es evidente que los coches tienen que cumplir con las funciones de poder albergar a los policías y estos a su vez poder hacer los movimientos correspondientes para que puedan atender a la seguridad ciudadana y eso creo que nadie lo ha puesto en cuestión y que por lo tanto tampoco hay una cuestión política es que además

ante un problema pequeño en un sitio muy grande pero bueno las cosas son así pues

jaun andreok eguerdi on guztioi debatimos en este punto del orden del día una moción del grupo popular consecuencia de interpelación

y con el debido respeto al legítimo derecho de cada grupo parlamentario a elegir los temas a tratar en el pleno no tiene mucho sentido

tras la recepción de toda la documentación y las explicaciones de la señora consejera se pretende solucionar un problema técnico sobre el que se lleva meses trabajando y que ya está en vías de solución

y qué se ha hecho y qué se está haciendo para intentar solucionarlo ertzaintzaren eta miñoen parke mugikorra berritzeaz dihardugu itxarondako eta eskatutako gauza bat de un parque móvil de dos mil trescientos vehículos del

en los últimos tres años casi la mitad el problema que hoy nos ocupa se centra en los ciento cincuenta vehículo

y sin menospreciar este número hay que tener en cuenta que en dicho parque móvil hay vehículos para atender todas las necesidades y todas las circunstancias personales hablaba usted señor ruiz de arbulo de los miles de agentes que pasan cientos de horas al mes montados en esos vehículos pues sabe usted de esos miles de agentes

por este motivo noventa y ocho quejas individuales de unos siete mil quinientos agentes actualmente en servicio el uno coma tres por ciento egun zerbitzua ematen duten

del llamamiento realizado por el sindicato mayoritario no parece o sí lo parece indicativo de la acogida de la mayoría de los y las

sabe usted también que la distancia que hay en estos vehículos entre la cintura del conductor o conductora y el embrague y el acelerador es apenas dos centímetros más corta

adquiridos a finales del año dos mil once y cuya adquisición y uso no ha generado problemas dice usted

decía usted creo en la interpelación que estos vehículos son peligrosos para la salud de los trabajadores que lo dice la inspección de trabajo en el informe provisional yo tengo el informe provisional y el definitivo y me gustaría que en el segundo turno me diga la página

señor ruiz de arbulo que son peligrosos para la salud de los trabajadores sabe usted también porque lo tiene

en el pleno de tres de mayo que el estudio ergonómico realizado por personal externo del departamento de seguridad en base a las prestaciones de los nuevos coches y la dotación de los elementos de seguridad que incorporan tanto activos como pasivos los califica como vehículo de excelencia vehículos de excelencia al criterio que usted ha expuesto aquí hace unos minutos de que esos vehículos no son óptimos su

criterio no sé el conocimiento que tiene en materia de prevención de riesgos laborales

es el mismo modelo que la guardia civil ha adquirido doscientos cuarenta y nueve vehículos recientemente y deja claro este informe que todos los problemas identificados en el seat léon se encuentran en el rango de un ligero

término que hace referencia a esa incomodidad a esa molestia que califica como riesgo tolerable riesgo tolerable convendrá conmigo que no es fácil conciliar las exigencias de la operatividad policial con las condiciones de seguridad física higiénica y ergonómica de usuarios y usuarias

león se debe a que llevan un habitáculo para personas detenidas o presas

y en este sentido como también le mencionaba la señora consejera hay que tener en cuenta que entre el personal de protección ciudadana que es susceptible de utilizar esos vehículos concretos hay apenas doscientos personas doscientos personas apenas que superan el uno coma ochenta y siete

de altura esta es la dimensión real del problema al que por supuesto al que por supuesto sin ridiculizar

nos gustaría poner en valor la amplia experiencia de los órganos de contratación del departamento de seguridad en esta materia pliegos que han sido referencia en el sector los vehículos estos ciento cincuenta y los otros trescientos veintiocho fueron contratados mediante un procedimiento público de acuerdo a un pliego de bases técnicas que debían cumplir

donde se volcaron las mejoras que debían reunir basadas en la experiencia de adquisiciones anteriores y derivadas del uso de esos vehículos y elaboradas con la aportación de mandos agentes servicios técnicos y área de mantenimiento y talleres

en el boletín oficial del país vasco y en el boe y a pesar de haber sido tratado también el tema de la renovación del parque móvil en distintas reuniones de los órganos paritarios del departamento nadie recurrió esos pliegos de condiciones esos pliegos de contratación como decía el señor prieto

fue tras la finalización del proceso de contratación y la recepción en julio del pasado año de los primeros vehículos

cuando llegaron las primeras quejas sindicales en aquel momento se quejaban porque esos vehículos carecían de mampara posteriormente en el mes de octubre con la llegada de ciento cincuenta coches patrulla con mampara llegaron las nuevas quejas sindicales

el departamento de seguridad contrató en el mes de octubre la realización de un estudio ergonómico externo al que me he referido anteriormente que además de las conclusiones mencionadas establece una serie de medidas y actividades para eliminar o reducir los riesgos

a que es un todo indisoluble las organizativas y las técnicas por tanto aquí si se trata de ridiculizar usted con el tema de los estiramientos sacándolo de un conjunto de medidas pues es quien está tratando de ridiculizar tras la denuncia sindical como bien decía en el mes de marzo hubo un requerimiento provisional de la inspección de trabajo

llegó el requerimiento definitivo de inspección de trabajo que se recibió

y que establece un plazo de seis meses para adaptar aquellas medidas técnicas

y dice para garantizar que en el transporte de las personas detenidas no haya riesgo para la salud ni para la seguridad ni de los conductores ni de las personas que se trasladan es decir hay que buscar ese equilibrio entre la operatividad policial y el resto de cuestiones que antes también mencionaba y también plantea que se adopten medidas organizativas

y el sentido común y que ya se están adoptando decía que el estudio dice además de poner en valor con respecto al vehículo anterior

importantes para usted no son óptimos destaca veintisiete puntos fuertes y diez puntos débiles este estudio

del parque móvil de la ertzaintza incluidas las furgonetas fabricadas en gasteiz y también en estas furgonetas hay puntos fuertes y puntos débiles no conocemos

entendemos que el vehículo tiene como dice el informe un ligero inconfort un riesgo tolerable y que hay que trabajar para solucionarlo y para aminorarlo

y por último en lo que se refiere al derecho de los trabajadores de ser consultados para la adopción de decisiones relativas a la organización del trabajo en la empresa

que esta pudiera tener para la seguridad y salud de los trabajadores por la elección de equipos de trabajo en este caso los vehículos policiales

se ha tratado la renovación del parque móvil en varias ocasiones tal y como consta recogido en las actas correspondientes de veintidós de febrero y diecisiete de octubre del pasado año y trece de febrero del presente tal y como le comentó la señora consejera se trata de una situación nueva que no tiene precedentes nunca antes la compra de vehículos había ido al comité de seguridad y salud laboral

el departamento estudiará el modo de mejorar el ejercicio de dicho derecho salvaguardando las garantías exigidas en los procesos de contratación pública y termino

a pesar de que el discurso no evidencia

y ha sido fácil llegar porque lo que exige realmente es en primer lugar que se dé cumplimiento a los requerimientos realizados al departamento de seguridad por la inspección de trabajo lo cual evidentemente lo inste o no lo inste este parlamento lo tiene que hacer el departamento

el señor ruiz de arbulo es que en el plazo determinado por el requerimiento él en su propuesta inicial planteaba en tres meses lo cual era inviable lógicamente pero en el plazo determinado por el requerimiento seis meses se remita al parlamento un informe exhaustivo sobre las medidas preventivas técnicas y organizativas adoptadas que resulten procedentes y viables para garantizar que estos vehículos seat león no supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores por lo tanto

agradeciendo la predisposición a llegar al acuerdo no tanto con el discurso del señor ruiz de arbulo

eskerrik asko mahaiburu andrea egunon guztioi hoy nos toca debatir sobre una moción del grupo popular relativa a la renovación

para empezar es importante repasar cómo hemos llegado hasta aquí porque estamos ante una mala gestión del gobierno vasco y es importante conocerla y reconocerla

una situación que impacta fundamentalmente en las condiciones laborales de salud

tanto de los agentes como de la ciudadanía y que la solución va a suponer además un gasto extraordinario elevado en enero de dos mil dieciocho se anunció que por fin se resolvía la renovación de los vehículos

se había comprometido a su renovación en el año dos mil quince finalmente se adjudicó por treinta y siete millónes de euros el suministro

tal y como se podía leer en la prensa los contratos adjudicados el cinco de enero de dos mil dieciocho tienen una vigencia de cinco años y a ellos pujaron varias empresas del sector finalmente se resolvió a favor del banco santander que suministró los todoterrenos por un importe máximo de trece coma dos millónes de euros

con un coste de veinticuatro millónes es decir cada coche sale por ochenta mil cien euros y cada cuatro por cuatro por ciento treinta y dos mil euros

los gastos de equipamiento policial y el mantenimiento hasta dos mil veintidós en julio de ese mismo año la consejera de seguridad visitaba las instalaciones de erandio para dar la bienvenida a los nuevos vehículos

de la propia consejera y que fue distribuido por la página del gobierno vasco se afirmaba que era la primera entrega de un amplio proceso de renovación del parque móvil

se completaría con otros ciento cincuenta vehículos con distintivos

al poco tiempo de recibir y comenzar con el uso de los vehículos se detectó

reducían notablemente el espacio en la parte delantera y en la trasera en febrero de este año supimos a través de un artículo del diarioes que la división de prevención y salud laboral

un informe externo de evaluación ergonómica del vehículo

por los sindicatos soluciones que proponía este informe gastar más dinero en modificar las mamparas

de calentamiento previos o la incorporación al trabajo incluso se hablaba de descansos posturales cada veinte o treinta minutos como vamos a comentar más adelante el documento enumeraba otros aspectos a mejorar como el espacio interior restringido en caso de que sea una unidad con módulo para detenidos

dificultoso y que no contaba con condiciones adecuadas para el almacenamiento seguro en su interior de porras armas y otros elementos necesarios para la actividad policial además proponía medidas muy diversas y algunas llamativas para solucionar los numerosos problemas

diez centímetros para las rodillas del copiloto o un cambio de asiento por uno más pequeño reconvertir la parte trasera para que la mampara solo fuera de una plaza

pudiera ajustarse como un automóvil normal limitar o restringir su uso para funcionarios de tallas extremas

o suspender como ya les he dicho veinte treinta minutos la labor policial para hacer descansos posturales también se aludían otras medidas de tipo organizativo tales como dar la posibilidad de elección de modelo de coche

ni de quien asumiría este coste dado que los vehículos no son de propiedad de la administración hay que subrayar que los coches cumplen con las características marcadas en el contrato por el propio departamento de seguridad en marzo de dos mil diecinueve

por las condiciones de los vehículos y también porque el departamento de seguridad realizó en el proceso sin la participación de la representación de las y los trabajadores el requerimiento definitivo que la inspección de trabajo le realiza el gobierno vasco es claro deberá adoptar las medidas preventivas técnicas u organizativas que resulten

y deberá respetar los derechos de participación y consulta de los representantes legales de las trabajadoras en la elección de los equipos de trabajo en definitiva desde elkarrekin podemos estamos de acuerdo con la motivación de este asunto las malas condiciones de los seat león recientemente adquiridos como vehículos oficiales

que tal y como acabamos de relatar es algo contrastado y que ha sido motivo de sucesivas noticias

se une a otras compras realizadas bajo la responsabilidad del pnv para policías especialmente para la policía local de bilbao donde se anteponen los criterios economicistas a los requisitos y condicionantes de los elementos a comprar aunque luego resulten más caros con tantos problemas y consecuencias

tarde y mal con apaños y sin participación de la parte social específicamente de los agentes sindicales

por todo lo que hemos expuesto desde nuestro grupo parlamentario entendemos que existen razones y argumentos para votar a favor de la iniciativa que hoy nos ha traído a esta cámara el señor ruiz de arbulo y de la enmienda transaccional

los partidos que sostienen al gobierno si bien nos gustaría realizar algunas consideraciones

es imprescindible respetar el derecho de participación y consulta de los representantes legales de las trabajadoras así como otros elementos profesionales

se trata de una manera de entender la gobernanza pública una gobernanza en abierto se ha de contar con la representación sindical esta

porque nada lo impide y es mucho mejor tampoco es una parte que ralentice o entorpezca el procedimiento que en este caso además ha sido todo un despropósito

y que se puedan realizar de forma ágil pero para nosotras hay que tener en cuenta que la participación y consulta ha de ampliarse a asociaciones y organismos interpelados en el asunto

van policías pero también personas detenidas y otras de hecho son las condiciones del habitáculo para las personas detenidas las que alteran las características en mayor medida influyendo también otras como los problemas de los asientos para el cinturón con el arma y otros dispositivos

etcétera esta parte para traslado de detenidas y detenidos tiene que consultarse con entidades que promueven los derechos humanos y que cuidan de las condiciones de las personas detenidas como son el ararteko fundaciones asociaciones varias y las propias universidades coherentemente con lo anterior

haber incluido las garantías de las personas detenidas o no que pudieran utilizar estos vehículos traslado de víctimas de menores etcétera además

medidas no tanto ordenadas sino dispuestas para un correcto servicio garantizando las diversas condiciones de uso

y atendiendo a las estipulaciones debidas para la salud y seguridad laboral

de una evaluación del proceso seguido para sobre todo un auténtico aprendizaje de lo sucedido y que no haya una repetición y por supuesto que ese

como en el propio parlamento y además que lleve y que conlleve

propuestas de mejora junto al detalle de responsabilidades si las hubiere

instrumento sobre todo evidentemente si se hace de una forma independiente

en definitiva nosotras votaremos a favor de la propuesta

al no haber presentado enmienda de totalidad a la propuesta del grupo popular despejada la curiosidad también he de confesarles que no me he llevado ninguna sorpresa

y esto cómo se lleva a cabo señora ubera señora garcía lógicamente con recursos económicos con recursos económicos de todos y todas como usted decía con un importante esfuerzo inversor

donde se preveía iniciar el procedimiento de licitación para la renovación de estos cuatrocientos setenta y ocho vehículos cuál fue el planteamiento de unos y de otros

pero también es cierto que elkarrekin podemos no aprobó aquel presupuesto con lo cual si de ellas y ellos hubiese dependido hoy no se hubiera renovado dicho parque móvil respecto a eh bildu ayer en la comisión de instituciones seguridad y gobernanza pública

andando y que durante años he visto cuál es su cacareado modelo policial y se ha visto con palabras y con hechos y en esta materia también se ha visto

donde se recogían esas partidas presupuestarias mientras nosotros planteábamos iniciar la renovación de esos cuatrocientos setenta vehículos finalmente cuatrocientos setenta y ocho para mejorar notablemente la situación del parque móvil de la ertzaintza ustedes qué planteaban además de otras mil oraciones importantes planteaban reducir casi el ochenta por ciento el presupuesto para el arredramiento de vehículos

y recambios son un cuarenta y cuatro por ciento y en un cien por ciento la adquisición de vehículos para la renovación de la flota eso es dotar de medios

y también los presupuestos dos mil dieciocho entonces mientras ustedes insisten en que la ertzaintza no cuente con medios imprescindibles para realizar su tarea de salvaguardar la seguridad de todos y todas nosotros queremos una policía formada preparada moderna

y de los bienes personales y colectivos y por otro lado está la cuestión de los derechos a la salud

precisamente ayer también en esa comisión de instituciones seguridad

votamos el informe de la ponencia para la aprobación de la quinta modificación de la ley de policía y algunos intentaban darnos lecciones de coherencia y congruencia pero como decía el movimiento se demuestra andando y dentro de esa reforma

señora garcía dedicado a la salud y protección y en concreto los artículos

estos temas los cuales fueron mejorados con las enmiendas de adición del grupo popular

votar en contra de la modificación de todo también de esos derechos de los trabajadores y trabajadoras podían haber solicitado la votación separada por estos artículos pero ustedes son muy maximalistas entonces todo está mal también esto y respecto a lo que decía en concreto

de la señora garcía cuando decía que la solución va a suponer un gasto excesivo también eso sí lo sabía del modo de actuar de la señora garcía y de algunos de los portavoces de elkarrekin podemos que decía supimos

ya sabemos de qué fuentes beben ustedes y por tanto pues no nos extraña luego saca algunas medidas del informe ergonómico

pues el informe que no sé si se lo ha leído habla de una serie de medidas

forman parte de un todo indisoluble todas también los estiramientos señora garcía y luego me ha sorprendido porque ha hecho una serie de consideraciones denominaba usted o matizaciones como respetar el derecho de participación que es imprescindible

porque si lo ha presentado a mí no me han dado traslado yo creo que esa es la forma de incorporar lo que usted pretende a

en esta cámara y la señora ubera decía que es más simple hacer las cosas bien por supuesto el que hace se puede equivocar el que no hace nada es imposible que haga las cosas ni bien ni mal no se va a equivocar nunca y este contar con los trabajadores también quizá la mayor novedad en este caso en este punto pues y es agradable escucharlo es por primera vez yo veo la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ertzaintza que

desde parece que desde eh bildu son trabajadores diferentes al resto de funcionarios bueno por lo menos también aquí

esos derechos me decía que he leído la interpelación de la señora consejera bueno he leído la interpelación de la señora consejera como la ha leído usted y he leído más cosas

para este tema que para un tema de educación que para cualquier otro tema de los que usted habitualmente nos suele